onu mujeres con motivo de este veinticinco aniversario ha puesto en marcha la iniciativa generación igualdad por los derechos de las mujeres y un futuro

donde está reuniendo a las próximas generaciones de activistas en favor de los derechos de las mujeres con las defensoras y los defensores de la igualdad de género y las personas visionarias que fueron indispensables en la creación de la plataforma de acción

la agenda más importante aprobada a escala mundial en favor de los derechos y el empoderamiento de las mujeres behin euskadik bat egiten duela

mundial de las mujeres de beijing su objetivo principal es que la cadena a favor de la igualdad

no se rompa su reto es que el legado de aquellas mujeres

el avance de la igualdad en el futuro pretende reunir a las próximas generaciones de activistas por los derechos de las mujeres con personas que tuvieron un papel fundamental en la creación de la plataforma de beijing como saben

que emakunde impulso en la sociedad vasca y en sus instituciones desde entonces cada decisión estratégica que se ha tomado en el terreno de la igualdad en nuestro país ha ido acorde con los avances de la igualdad en el contexto internacional una alineación internacional

ya que cuando hablamos de desigualdad de violencia contra las mujeres estamos hablando de un problema a nivel mundial que si bien se manifiesta en diferentes grados y maneras tiene el mismo origen y por tanto necesita respuestas similares en euskadi con el impulso de emakunde queremos aprovechar el marco que nos ofrece generation equality para dar un paso más como país en nuestro compromiso con la igualdad

un pacto social y ciudadano por la igualdad y contra la violencia machista en euskadi la igualdad es un trabajo en equipo nadie puede quedarse fuera de este compromiso

desde igualdad justicia y políticas sociales del gobierno vasco vamos a hacer un llamamiento a todos los agentes sociales vascos para que den un paso más en su compromiso con la igualdad vamos a poner a disposición de ellos los instrumentos metodológicos que nos ofrece generation equality esta metodología ya se ha testado en euskadi emakunde

y también con los representantes del consejo vasco de la juventud vamos a proponer a los distintos agentes un itinerario pautado y basado en los principios de beijing para que puedan hacer un diagnóstico interno

en igualdad en su ámbito o institución durante los últimos veinticinco años y podrán visualizar los avances a los que se comprometen en el futuro

ahalbidetuko duten dinamikak sortzeko comunicaremos esta iniciativa en un acto que se celebrará el próximo veintiséis de abril

delako nos gustaría para ello contar también con la complicidad implicación de los grupos de este parlamento en el terreno de la igualdad aún queda

solo a través de esta transmisión de generación en generación podremos seguir

porque queremos que la nueva generación sea la generación de la igualdad eskerrik asko

comunicación clara medidas claras mensajes claros y coherentes

tratando de extraer aprendizajes analizando todas las prácticas internacionales adoptando decisiones que varían

de la misma manera que en alemania francia italia austria reino unido o china taiwán corea del sur o nueva zelanda por referencias utilizadas

que tiene certezas absolutas no hay certezas absolutas y en cada reunión profesionales de diversas disciplinas y responsables políticos nos preguntamos qué podemos mejorar y encontramos margen de mejora todos los días zentzu honetan iriarte andrea bai

un año de improvisaciones y de olas que nos atrapan una detrás de otra ningún cambio estructural ni respuesta que haya ido más allá de restringir o echar la culpa a la ciudadanía mire salga a la calle póngase en la cola de la farmacia o en la de la carnicería o siéntese en una terraza

sus compañeros de formación política en el congreso de los diputados no han votado a favor de la prórroga del estado de alarma usted en qué pueblo cree que vivo usted en qué pueblo

cada uno de los consejeros consejeras o sus familiares y sus allegados

para no saber lo que piensa el pueblo o lo que no siente el pueblo no cree usted que no venimos aquí todas las semanas para escuchar todas las cosas que escuchamos

la respuesta social debe mantenerse y este próximo sábado es también un día señalado tenemos la experiencia de la final anterior de la itzulia de la interacción social en san josé o en semana santa y posteriores

unidad de convivencia habitual la prioridad es cumplir las medidas en favor de la salud personal y la salud pública

es y tiene que ser la mejor garantía para superar esta situación

dentro del contexto de los objetivos programados por su departamento para la presente legislatura usted como consejero de planificación territorial vivienda y transportes

de movilidad sostenible cuyo propósito principal consiste en establecer un marco para impulsar la movilidad sostenible en euskadi

la interoperabilidad de los títulos de transporte y la promoción del transporte ferroviario entre otros

tiene su origen en un anterior proyecto de ley que decayó como consecuencia del fin de la pasada legislatura

la prioridad es clara realizar un planteamiento integrado y multimodal que responda adecuadamente a las necesidades de la ciudadanía en materia de transporte de personas y mercancías generar un modelo de movilidad que contribuya a reducir o minimizar el impacto de carácter ambiental y social que se deriva del modelo de transporte actual promover alternativas de transporte a los hábitos actuales de la ciudadanía que sean menos contaminantes

de forma integrada dotar a las administraciones de herramientas de planificación en materia de movilidad sostenible que entre otros reduzcan de forma drástica la contaminación en las ciudades derivada del transporte poner en marcha medidas tendentes a reducir las emisiones y evitar la urbana fomentar el uso de energías renovables en el transporte pero sobre todo

en todo caso una red de transportes adecuada a las necesidades de movilidad de la población en su conjunto un transporte eficiente atractivo accesible económicamente integrado en todas sus modalidades un transporte en época presente del mismo modo el mencionado anteproyecto de ley que en breve será remitido a esta sede para su tramitación recoge además de lo que se ha señalado una serie de novedades y mejoras en relación a la anterior propuesta

recoge el nuevo anteproyecto de ley de movilidad sostenible sobre el cual ya trabaja su departamento eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna erantzuteko

el anteproyecto de ley de movilidad sostenible establece un marco para impulsar la movilidad sostenible en euskadi

activa el impulso del transporte público frente al vehículo privado

de los títulos de transporte público en un sistema integrado intermodal el impulso del enfoque de movilidad sostenible desde el urbanismo en los municipios

ferroviario su articulado se basa en el proyecto de ley

de la pasada legislatura y desde entonces

hemos incorporado al contenido novedades que incluyen derechos y obligaciones de la ciudadanía la participación de la ciudadanía en la elaboración

de sus actuaciones urbanísticas esto supone en la práctica

y de seguridad vial en el diseño de las calles y espacios públicos el nuevo texto

el fomento por parte de las administraciones competentes de aparcamientos disuasorios en la periferia urbana conectados público el anteproyecto de ley añade también una disposición adicional primera en la que se recoge la creación de la agencia de seguridad ferroviaria de euskadi un ente público de derecho privado en base a los estándares europeos y la normativa vigente en el ámbito internacional

por medios ferroviarios sus funciones serán velar por el mantenimiento de la seguridad en la circulación mediante la supervisión

de los diferentes actores en esta materia y la definición de los objetivos de seguridad el impulso del transporte público es uno de los ejes para la movilidad sostenible y en este sentido

un sistema tarifario único e integrado en euskadi la apuesta por la interoperabilidad de los títulos existentes en todos los modos

se emitieron diecinueve millónes de toneladas de ce o dos en euskadi una cifra un tres coma siete por ciento inferior al año anterior pero

correspondió al transporte la ley de movilidad sostenible precisamente pretende avanzar hacia la reducción de la huella de carbono

que priorice el acceso de las personas al transporte público y en ello estamos hace dos semanas

que da inicio a la tramitación del anteproyecto y a partir de ahora y antes de pasar

el borrador se someterá a las consultas audiencias e informes preceptivos

y participación pública la previsión es que el texto definitivo pueda ser aprobado por el consejo de gobierno

el gobierno vasco renuncia a buscar gas en álava al constatar que no podría

porque no podía extraerlo es decir que renuncian a la

por el trabajo que los movimientos ecologistas y los movimientos sociales están haciendo para parar este tipo de actividad y renuncian gracias a que se ha aprobado por fin una ley liderada por cierto por la coalición a la que pertenezco es esta ley es este movimiento ciudadano el que ha conseguido pararles los pies y bajarles los humos porque si por ustedes fuera el gas seguiría

a todo gas porque es verdad que desde luego han hecho todo lo posible para que esto no sea así

esta ley para descafeinar esta ley en el congreso han presentado hasta cuarenta enmiendas

una que tiene que ver con regalar millónes

emisoras de ce o dos de esto hablaremos en otra ocasión pero digo

porque en realidad estas enmiendas iban dirigidas a que siguiera existiendo a que siguiera pudiéndose explorar y explotar el gas en euskadi a pesar de que lo del gas

esta esta política energética que pretendían llevar a cabo no tenía ningún sentido por razones ecológicas y porque también estaba tramitándose esta ley que lo iba

ustedes que suelen les gusta presentarse a sí mismos como muy buenos gestores decidieron

incluyendo despilfarrar veinte millónes de euros para y en medio por cierto de una crisis sanitaria y económica terrible despilfarrar veinte millónes de euros

para saber si hay gas o no en subijana ha tenido que venir esta ley
para que por fin hinquen la rodilla eskerrik asko gorrotxategi andrea denbora agortu da erantzuteko

seguir íntegramente la nota emitida por el gobierno vasco

y la enmienda que se haya podido aprobar supongo que esa que se imputa al partido nacionalista vasco se habrá aprobado también con los votos de su formación política

erabakiak hartuko ditugu el catorce de marzo de dos mil diecinueve el parlamento europeo respaldó el objetivo de la unión europea

descartada la explotación de gas en euskadi es necesario acelerar la ejecución de instalaciones de energías renovables

y mantenemos para esta legislatura nuestros dos objetivos de país lograr que en dos mil veinticuatro la cuota de energías renovables

y reducir en un treinta por ciento la emisión de gases de efecto invernadero seremos capaces de ayudar todas y todos en la misma dirección

mantenemos también el objetivo de reducir la emisión en un cincuenta y cinco por ciento para dos mil treinta

en el que estamos avanzando antes y después de esta ley euskadi ha recorrido un camino previo a esta ley y lo vamos a mantener

se incorporó el cambio climático como una de las prioridades de actuación de estrategia ambiental de desarrollo sostenible hace trece años aprobamos el plan vasco de lucha contra el cambio climático

hace dos años aprobamos las directrices de ordenación territorial incorporando la perspectiva climática

nos hemos comprometido en aprobar en consejo de gobierno en esta legislatura una nueva ley de transición energética y cambio climático cuyo anteproyecto ya hemos empezado a tramitar y hemos procedido a la tramitación del plan territorial sectorial de energía eólica para cumplir los objetivos

las renovables son nuestro objetivo con el gas como elemento de transición como lo hemos venido diciendo desde que en euskadi nos empeñamos en la construcción de toda la red y como hemos venido explicando las obligaciones adquiridas ante la posibilidad de existencia de gas sin que nos viéramos exclusivamente dependientes del exterior en todas las décadas que serán de transición señora gorrotxategi

el panorama al que nos enfrentamos los vascos con la pandemia no acaba de mejorar al contrario hoy casi todos estamos confinados hemos retrocedido semanas por el repunte de casos un repunte que nos mantiene entre las comunidades con peores indicadores pese a las restricciones

y lo que les diga desde las instituciones gubernamentales no son certezas ni voluntad de sumar

decenas de miles de vascos pendientes de la segunda dosis en una especie de limbo

no sabe qué hacer y no hacen nada para evitar que esas personas hoy se sientan como conejillo de indias ante esta situación no sabemos qué opciones manejan ustedes aparte de esperar

desde el partido popular y ciudadanos que den la posibilidad de vacunarse con una segunda dosis de astrazeneca

y mientras tanto las recetas de siempre no apoyan reformas legales para después del estado de alarma lehendakari pero quieren prorrogar el estado de alarma y pedro sánchez se ríe y de qué manera cuando las comunidades piden un marco seguro de actuación su socio el señor sánchez ha perdido un año sin preparar este momento

y también como siempre la hostelería pagando el pato solo se les permite terrazas limitación de horarios y limitación de aforos ni media ayuda más

cómo valora usted la preocupante evolución de la lucha contra la pandemia aquí en euskadi eskerrik asko iturgaiz jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

desde el primero de los días cada ola y cada pico son preocupantes

hace trece meses afrontamos una primera ola con datos extremadamente alarmantes fue necesario un confinamiento domiciliario de tres meses no el que usted dice la ocupación uci en euskadi llegó a alcanzar hace trece meses las doscientos treinta y dos camas el día dos de abril a mediados de julio se inició una segunda ola

los días trece y catorce de noviembre la ocupación uci en euskadi alcanza las ciento cuarenta y seis camas doscientos treinta y dos

su máximo en seiscientos sesenta y siete casos unos días más tarde la ocupación uci en euskadi hasta las ciento setenta y tres camas ahora nos encontramos en la tercera subida de esta segunda ola la tasa de incidencia acumulada ha alcanzado en euskadi los cuatrocientos cincuenta casos

euskadi como otras comunidades o países estamos logrando mejorar la respuesta y resultados ante cada nueva oleada comparativamente con las anteriores

de la constatación de la situación y de las medidas cambiantes que se adoptan en andalucía en castilla león en galicia en madrid o en murcia nos encontramos en la misma situación

de competición sino de colaboración como creo honestamente que hemos procedido el lehendakari y algunos presidentes también pertenecientes al partido popular eskerrik asko

lehendakari yo le constató la situación de aquí y la situación de aquí es que su gobierno es un desbarajuste

y su socia la señora mendia negándose a ese respaldo valoraciones suyas triunfalistas o negar la realidad usted dijo hace pocos días que euskadi

en peor posición que otras comunidades usted lo dijo se acordará y la autocrítica lehendakari para decir eso porque alguna responsabilidad tendrán ustedes

mire veamos algunos puntos que yo le he dicho anteriormente de eso que

nosotros hemos propuesto vacunaciones voluntarias con la segunda dosis de astrazeneca

hay personas que no quieren sentirse cobayas pero también hay ciudadanos vascos que quieren su dosis su dosis segunda su segunda dosis voluntariamente

profesores sanitarios que han sido vacunados de la primera

con ellos sería bueno tener una respuesta rápida de este gobierno porque decenas de miles de vascos podrían salir de ese limbo limbo por cierto en el que también están los octogenarios nacidos en mil novecientos cuarenta y uno que no se les está vacunando que no han recibido llamadas para vacunar no sé si problemas informáticos o lo que sea le hemos propuesto que se vacune usted mismo para dar ejemplo como tantos dirigentes mundiales que lo haga públicamente nos han dicho que cuando les toque pero no le toca a nadie del gobierno

porque es llamativa la prisa que se dieron en llamar a la televisión para grabar vacunaciones irregulares de sus afiliados oiga

que la televisión transmita con confianza y además déjese

otras comunidades autónomas están mejor o en cifras parecidas a las nuestras con la hostelería funcionando y usted lo sabe

horarios aprendamos de madrid quédese con lo bueno lehendakari

al virus que mantenerla abierta y preparen bien el dispositivo de bilbao para la final de eskerrik asko iturgaiz jauna

para no intentar entrar al trapo de tantas barbaridades que dice usted

señor azpiazu usted se ha vacunado si por qué no se hace usted las preguntas que aquí me plantea a mí en las comunidades en las que usted

o quiere que le saque yo todos los datos de las comunidades que usted preside

mire señor iturgaiz una actitud positiva es deseable y sería beneficiosa para la sociedad insiste en su línea de descrédito con las vacunas

mire usted ha recomendado que yo me vacune para qué para luego acusarme de vacunación irregular ya llegaremos al mismo lugar y llegaremos todos a la vez y le responderé con datos objetivos hemos administrado quinientos ochenta y siete mil vacunas con la estrategia de reserva a medida que se ha visto como acertada un total de cuatrocientos veintisiete mil personas han recibido ya una primera dosis

la vacunación representa la mejor noticia para nuestra sociedad y en cuanto al estado de alarma mantengo el mismo criterio necesitamos seguridad jurídica plena para nuestras decisiones es fundamental limitarnos en la movilidad y la interacción social reducir la burbuja de relaciones y mantener la distancia

de decisiones sino en la seguridad jurídica de las decisiones que tomamos señor iturgaiz mis planteamientos son claros eskerrik asko eskerrik asko

buenos días lehendakari presidenta miembros del gobierno parlamentarias

estos días estamos viéndole mendigar en madrid un estado de alarma que le permita seguir haciendo aquí a su antojo tomando decisiones sin sentido improvisando mendigando al señor sánchez lo que el señor erkoreka tachó en su día de ciento cincuenta y cinco no anunciado

si por ejemplo las calles son de todos solo hasta las diez o lo son durante todo el día esas cosas que usted lleva meses manejando con tremendo éxito y a los datos me remito

liderando el pelotón en velocidad de extensión de la cuarta ola con un reducidísimo porcentaje de la población vacunado intercambió cromos con el gobierno español su voto a favor de sucesivos estados de alarma para que le dejarán convocar elecciones y en noviembre respaldó que el tándem sánchez iglesias se lavasen las manos y delegasen en las comunidades autónomas

ya era suya usted feliz y los ciudadanos vascos desesperados y desde entonces ha contribuido con su buen hacer a este liderato del país vasco

ha hecho de la diferencia su principal criterio de actuación

para no parecernos en nada a esas comunidades autónomas que hoy respiran bastante más aliviadas eso sí la culpa de todo es de una ciudadanía irresponsable que se salta sus restricciones

y si la culpa no es de la ciudadanía irresponsable es de un gobierno español que niega al gobierno vasco ese mando único para esto y para todo lo que con tanto ahínco persigue sin rubor recurre a los partidos que soportan al gobierno para que presenten de urgencia una proposición de ley antipandemia

normal y garantista una proposición de ley para blindarse del control judicial que ha osado llevarle la contraria para enorme satisfacción del sector hostelero que en los jueces han encontrado el oxígeno que usted tenazmente les niega porque sí opacidad improvisación

es esto lo que plantea seguir haciendo a partir del día diez de mayo y si no es eso

ese paraguas que le ha permitido violar derechos fundamentales de las personas en los últimos meses

por esas sesudas opiniones dignas de cualquier barra de bar eskerrik asko martínez andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

doctora martínez sabe usted que la capacidad de articular medidas en euskadi está limitada por autos o respuestas anteriores del tribunal superior de justicia del país vasco

como son la limitación de movilidad la minimización de interacción social la estrategia prevista es

que adoptemos para preservar la salud pública nos gustaría además que el contexto permitiera que fuesemos operativos mire señora martínez hace un año

con legislación ordinaria suficiente para dar cobertura jurídica a las medidas no se abordó la adaptación de esta legislación y por lo tanto solicité el estado de alarma ahora en tanto en cuanto no se avance en la modificación de la ley de medidas especiales de salud pública de mil novecientos ochenta y seis considero necesario mantener la cobertura jurídica del estado de alarma ante la incertidumbre que vivimos la alternativa no puede ser la nada señora martínez y este es mi planteamiento en adelante seguiremos adoptando las decisiones que tengamos que

corresponde o tendremos que esperar a órdenes comunicadas y antes de emitir nuestros decretos

y a los sectores que potencialmente se sientan afectados necesitamos garantía jurídica y operativa eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

el estado de alarma en sus manos y en las de su colega sánchez es un estado de alarma

cierto que cada vez menos encubierto ninguno de los dos han demostrado estar a la altura de las circunstancias ambos han demostrado una inmunidad absoluta a la autocrítica hoy todos sabemos que dan igual los resultados lo que importa es el ejercicio del poder el modelo de control de aglomeraciones humanas del día de la final del athletic contra la real sociedad

no desplegar dispositivo alguno para evitar que sucediera lo que sucedió es ese su modelo de anticipación es su modelo de gestión de la pandemia

vox dice no a su estado de alarma al suyo y al de sánchez dice no a su autoritarismo y a su forma de gestionar esta crisis y cómo no un rotundo no

acelerada para seguir limitando los derechos de la ciudadanía vasca no hay un solo dato que le avale como el gestor adecuado de la pandemia que estamos sufriendo la crisis en sus manos señor urkullu es una pésima noticia para toda la ciudadanía vasca

el otro día un compañero parlamentario me llamaba comandante usted caudillo vamos subiendo en el escalafón pero que usted me hable de autoritarismo señora martínez mire nuestra estrategia complementaría

y consiste en desarrollar las siguientes iniciativas acuerdo y concertación con el gobierno español mediante interlocución bilateral también con las comunidades autónomas y en el consejo interterritorial de sanidad actualización del plan bizi berri su cuarta edición estaba prevista para junio y la adelantaremos a mayo contemplando el hipotético nuevo escenario sin estado de alarma

trabajar la articulación de medidas preventivas para un escenario sin la cobertura jurídica actual planteo también un acuerdo interinstitucional en el seno del consejo asesor de labi para adelantar un nuevo decreto de cara a anticipar el escenario previsible tras el nueve de mayo

que se encuentra en tramitación en el parlamento vasco esta es la estrategia prevista por el gobierno la seguiremos valorando analizando y actualizando cada día comparto

el conjunto de medidas restrictivas en vigor es severo desde el inicio de la pandemia se está consiguiendo que el pico de cada nueva fase ascendente sea más bajo que los anteriores señora martínez las medidas que se adoptan y el conjunto de la estrategia que se sigue

la sociedad ha de saber que su esfuerzo y el cumplimiento de todas las medidas y restricciones ofrece resultados así se lo reconocemos se lo agradecemos

entre tanto tenemos que garantizar la salud pública y las medidas que se han demostrado más eficaces son la limitación de la movilidad y la limitación de los encuentros

las medidas restrictivas se han demostrado eficaces para frenar la expansión de la pandemia no voy a criticar lo que no se ha hecho vamos a perseverar en lo que se puede hacer

es el estado de alarma eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

langileen alde pero sí vamos a hablar de euskaltel vamos a hablar de la empresa euskaltel y de la pérdida y desaparición de la empresa euskaltel como empresa vasca y como empresa independiente empezaré con unos números si se me permite el chiste fácil de teléfonos

esta empresa ha sufrido en los últimos tiempos el primer número va a ser una cifra modesta en comparación con otras que se van a exponer a lo largo de esta charla la primera cifra son doscientos cincuenta mil euros

es el total de la subida salarial que reivindican los trabajadores y trabajadoras de esta compañía en la negociación del último convenio

de subida para toda la plantilla una media de noventa euros por persona a esta subida la dirección les ha dicho que no después de dos años de salarios congelados

sí se puede permitir la empresa euskaltel setenta y cuatro millónes de euros en los últimos seis años en bonus para esa misma dirección el pan y la sal a la plantilla cuarenta y ocho millónes de euros que se repartieron por la salida a bolsa y veintiséis que se van a repartir ahora por la liquidación de euskaltel como empresa independiente

se podrían financiar tres siglos de coste de la subida salarial que ahora se les niega

este es un modelo de empresa señora tapia en esto es en lo que han convertido euskaltel usted la señora mendia ahora ausente y por supuesto el máximo responsable el lehendakari

esta es la empresa que han creado esta es a día de hoy su modelo de empresa

eta galera horren erantzukizuna eusko jaurlaritzarena da el gobierno vasco es responsable de la desaparición de euskaltel como empresa vasca

como empresa independiente porque en estos momentos euskaltel es simple y llanamente una filial de una empresa española y recordarán la serie

yo no voy a decir que esto sea muy divertido pero va a ser drama con banderas lo voy a explicar gráficamente para que se vea el proceso que ha sufrido euskaltel

y ahora euskaltel aunque alguno se piense que esto es la bandera de gasteiz y la haya puesto por algún sitio y todo es una empresa con

en el paraíso fiscal de la isla de jersey ese es el camino que ustedes

señora mendia han provocado de ser una empresa vasca de euskal herria a ser una empresa radicada en el paraíso fiscal de jersey porque este es el organigrama y este es en estos momentos el esquema

aquí está másmovil aquí abajo y a través de una serie de empresas interpuestas los propietarios son tres fondos de inversión estadounidenses

de menor tamaño que poseen a su vez una empresa que es propietaria del cien por ciento de másmovil que a su vez se hará probablemente con el cien por ciento de euskaltel

esa es la realidad ni arraigo ni sinergias ni empresas vascas ni red de fibra porque la red de fibra se ha perdido con el resto de la empresa la red de fibra

para precisamente financiar esta operación especulativa hau da errealitatea

yo tengo una serie de preguntas porque es verdad que el gobierno vasco ha apoyado todo este proceso pero también es verdad que en dos mil diecinueve hubo un punto de inflexión a consecuencia de la presión social y política a la que modestamente contribuimos y este gobierno

y empezó a hablar de la posibilidad de entrar en euskaltel aunque públicamente se decía que todo estaba bajo control no solo se empezó a hablar de la posibilidad de que el gobierno vasco entrara en euskaltel el gobierno vasco tomó la decisión de entrar en euskaltel

y se lo transmitió a la empresa y eso nos consta que es así no solo se aprobaron aquí en este parlamento declaraciones en ese sentido sino que la decisión estaba tomada

quién le impidió quién le vetó para entrar en euskaltel por qué no se materializó ese proceso de entrada en euskaltel nork

que no estaba tan mal en realidad pues bueno era un secreto a voces que todos los sectores preocupados por la economía vasca estaban realmente escandalizados porque lo que ha pasado lo que ha pasado no solo era previsible sino que lo que ha pasado estaba previsto

con pelos y señales cuando dijimos que el objetivo de zegona era poner a euskaltel en el escaparate cebarla y venderla para dar el pelotazo el mismo pelotazo que había dado

de consejero delegado los de zegona y era perfectamente previsible y ustedes parece ser que bueno se

y parece ser que en ese momento esa apuesta sí era viable ahora no sabemos qué ha pasado

como defensores de una operación en la que se desmantela euskaltel a másmóvil y nos dicen que ahora es imposible dar el bostg si no se está másmóvil

era posible qué habrá pasado en este último mes y pico cuando hace tres meses se está hablando de la antigua estrategia del se habían hecho acuerdos con orange para

con su red como se ha hecho en el pasado con la telefonía móvil y ahora resulta que no que esto o la nada y a mí me queda una duda

cuando defienden esta operación están mintiendo para ocultar su impotencia esa es la mejor opción ojalá fuera eso cierto o si realmente se creen lo que están diciendo

porque eso sería un mensaje aún más preocupante para un país que basa su tejido productivo
en las pequeñas y medianas empresas eskerrik asko casanova jauna erantzuteko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor casanova a la hora de exhibir ikurriñas podría haber exhibido usted

que todavía recientemente era el símbolo de una de las denominaciones precedentes de su formación política hasteko eta behin

euskaltel no desaparece podremos discutir sobre su integración en un proyecto más amplio de la mano de másmóvil

con otros agentes algunos de los cuales usted ha mencionado operadoras entidades financieras que pudieran haber estado analizando el plan de negocio de euskaltel

vamos a trabajar con los nuevos accionistas y contamos con un compromiso de cinco años de arraigo muchos años para trabajar y conseguir darles continuidad

no se consigue en términos de capital o de controles públicos el arraigo se garantiza desde la perspectiva pública

que sea atractivo para la inversión se consigue desarrollando proyectos conjuntos con el sector privado se consigue consolidando un mercado local que sea un eslabón clave en los resultados y el potencial de las empresas instaladas en euskadi y tenemos muchos ejemplos de multinacionales que llevan años en euskadi

en este espíritu de colaboración nos vamos a encontrar con másmóvil euskaltel estoy convencido y nos vamos a encontrar porque nos queremos encontrar euskadi tiene una apuesta decidida por la transición digital el despliegue de las redes bostg la inteligencia artificial y el desarrollo

la salud personalizada o el medio ambiente estamos avanzando según el informe de competitividad de orkestra para dos mil veinte euskadi ha alcanzado el séptimo puesto del índice europeo de digitalización casi diez puntos por encima de la media europea

conectividad capital humano uso de servicios de internet en los hogares

y euskadi se sitúa por delante de países relevantes como alemania francia o austria

en el nuevo plan de ciencia tecnología e innovación dos mil treinta hemos aprobado la estrategia para la transformación digital de euskadi dos mil veinticinco y vamos a invertir mil cuatrocientos millónes de euros vamos a reforzar el basque cibersecurity center

ancha ultrarrápida y el servicio metaposta nuestro programa recoge el compromiso del basque artificial intelligence center esa es nuestra apuesta por un ecosistema atractivo para la empresa

y vamos a seguir trabajando para que los fondos de las entidades de previsión y los inversores vascos participen en las empresas del país para fortalecer su arraigo

atendiendo siempre al marco regulatorio que condiciona sus inversiones desde dos mil nueve no estaría mal reconocer su esfuerzo en el marco de todas las entidades financieras también vascas existentes estamos abiertos a la nueva economía con realismo con inversiones y proyectos compartidos

esta es la inversión que hace el gobierno vasco esta es la vía para favorecer el arraigo de las empresas y la atracción de inversión

con un incremento del ciento sesenta y tres por ciento de la inversión extranjera en euskadi estamos hablando de un sector de telecomunicaciones abierto y global las inversiones van a ser multimillónarias y la competencia de las grandes empresas

y ante esta realidad la unión europea aboga por un mercado unificado de las telecomunicaciones esto va a exigir músculo tecnológico y financiero así como reducir la atomización empresarial actual hoy ya asistimos a anuncios de fusión entre telefónica

este proceso exige formar parte de actores relevantes en el mercado europeo

no en la primera división sino en la división de honor euskaltel por sí sola tenía dificultades para acceder a las inversiones necesarias en el escenario bostg euskaltel tiene mucho atractivo para los inversores

dado el sector de telecomunicaciones donde opera euskaltel junto a másmóvil tiene posibilidades de jugar en esta división de honor y eso será positivo para euskadi nuestra determinación es aprovechar esta oportunidad con un horizonte mínimo de cinco años para que este proyecto contribuya a impulsar

egun on berriro voy a leer una transcripción de

por el grupo de eusko alkartasuna voy a leer una parte en el año dos mil doce en relación a la venta que se propuso y que se materializó en su momento de la red y de las acciones del gobierno vasco

lo que propone el gobierno en definitiva es vender sus redes a un inversor externo e interesado también en la compra de euskaltel

pretende deshacerse de un gran paquete accionarial lo que unido a los planes del ejecutivo hace evidente del riesgo de que un inversor ajeno a la sociedad vasca se haga con el control de euskaltel

con lo que las decisiones estratégicas de la compañía responderían a intereses ajenos a los de este país que perdería así una firma comprometida con su bienestar y desarrollo económico año dos mil doce hemos vuelto a repetir este tipo de por cierto usted nos decía que siempre pensábamos en términos negativos

de dos mil doce y en cada uno de los mugarris a los que anteriormente me refería euskal herria bildu le ha advertido del camino que estaba tomando euskaltel y euskaltel no desaparece el otro día en una rueda de prensa traje a colación el final de un célebre el libro de umberto eco todo lo que nos queda de una rosa es su nombre

va a hacer desaparecer esa marca pero euskaltel sí desaparece como empresa independiente

de fondos de inversión y desaparece como empresa vasca porque entre las prioridades de euskaltel en ningún momento va a aparecer a partir de ahora a apostar de forma prioritaria por este país

ni por ninguna otra cuestión que no sea el máximo lucro posible que pueda prestar a sus propietarios a los dichos

negar eso es negar la evidencia usted hablaba de arraigo de arraigo

conseguido en base no solo a cuestiones legales o propietarias efectivamente puede haber formas de trabajar y de arraigar empresas con núcleos de decisión fuera que están aquí yo eso no lo niego

está blindado por los estatutos de la empresa está muy bien llevarse bien pero está muy bien también tenerlo firmado en un papel y eso es

de permanencia y además en esos cinco años están condicionados a que no cambie el accionariado de los propietarios

puede cambiar en cualquier momento porque ahí el contrato de pertenencia que tienen los fondos con másmóvil es de un año y cuando puedan pegar el pelotazo y revender másmóvil otra vez lo van a hacer y a partir de entonces la palabra dada no tiene ningún valor vinculante

no me ha dicho por qué decidieron entrar en euskaltel y luego no lo hicieron y tampoco me ha dicho en qué momento hay un análisis económico y técnico que diga que el proyecto anterior a la compra de másmóvil era inviable y evidentemente para seguir ofertando desarrollo tecnológico y bostg había que entrar en esa venta

y ustedes para no asumir la incapacidad de dirigir

que estén a favor sinceramente de este proceso y si hace falta aliarse con un grande porque no sé hacer otro tipo de herencias como se acababa de hacer una con orange para utilizar su tecnología de bostg o si hace falta entrar en un grande por qué euskaltel no coge

de un grande porque esto no es fruto de ninguna reflexión estratégica basada en las necesidades de este país sino que es una simple y pura operación especulativa

le están dando cobertura sí que ha cambiado mucho entre los años noventa y los años dos mil veinte las cosas en

que en ese momento ante un reto estratégico quiso dar una respuesta de país y ahora en estos momentos ante los retos estratégicos no tiene capacidad de generar respuesta propia ninguna y el mensaje que traslada al país es que somos demasiado pequeños para competir en el contexto internacional eso usted no se lo diría a orona

de un tamaño relativamente pequeño en el contexto global que lo están haciendo excelentemente bien y hay muchas empresas que en base a tener una amplia cuota de mercado

de kutxabank pueden competir con gigantes y hacer las cosas muy bien eso no es justificación eso es la misma justificación que nos da la derecha española más rancia para negar la viabilidad de nuestro pueblo como un estado soberano ustedes son demasiado pequeños para sobrevivir en el mundo globalizado quizás
el pnv lo piense pero desde luego euskal herria bildu no eskerrik asko casanova jauna

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor casanova no sé a quién se refería al decir que ustedes son demasiado pequeños si a la representación del partido nacionalista vasco porque si es así

dena den parece que usted no manifiesta una posición contraria a que euskaltel pueda formar parte de una entidad mayor

de una empresa mayor usted sabe lo que está diciendo sabe lo que está diciendo cuánto cuesta una acción de una empresa cotizada en bolsa

yo asumo que nuestras opiniones divergentes

es que utilice usted medias verdades para confundir a la sociedad por lo que me va a permitir señor casanova aclarar algunas de sus tergiversaciones interesadas uno

con un cuarenta por ciento de participación en su capital por lo tanto ni siquiera en sus inicios fue una sociedad pública del gobierno vasco el objetivo puede dar entrada en el capital señor casanova a socios privados así se hizo con el grupo mondragón

o telecom italia fueron socios privados

dos en dos mil doce el gobierno vasco junto con otros accionistas privados vendieron su participación en dos mil doce dos mil doce señor casanova

para dar entrada a socios inversores en el cuarenta y ocho coma uno por ciento del capital de euskaltel

euskaltel estaba valorada en más de cuatrocientos millónes de euros y la venta de la participación pública supuso una plusvalía para las arcas públicas

tres desde hace casi diez años el gobierno vasco no es socio de referencia ni tiene ninguna participación en el capital de la empresa desde hace casi diez años

octavo habla usted de riesgo para el empleo en realidad el empleo está garantizado los nuevos accionistas han dado su palabra

no tengo por qué dudar de la palabra del consejero delegado ni de la capacidad de la compañía para mantener e incrementar los empleos actuales termino con un mensaje en positivo porque estamos ante una oportunidad el gobierno vasco va a mantener una estrecha relación de colaboración con la nueva empresa vamos a comprometernos con el futuro de la nueva economía digital en euskadi

buenos días gracias presidenta lehendakari consejero consejeras consejeros señorías bien

del dramatismo y de la debacle de la iniciativa anterior

y por despejar dudas si eso puede ser algunas cuestiones ya se han tratado en la iniciativa anterior pero tenemos que decir que algunas cuestiones de esta operación pues han demostrado vuelvo a decir por la historia de euskaltel de cierta debilidad del gobierno vasco en asuntos económicos importantes últimamente

por todos los sitios de las telecomunicaciones vascas de nuestro tejido empresarial además los propósitos como

del gobierno vasco no eran muchos hace poco tiempo en relación

actuación normal en el mercado o una operación que se realiza frecuentemente entre actores económicos mercantiles entre empresas como esta pero la historia de euskaltel es distinta a la de otras empresas impulsada por la iniciativa pública una compañía a la sombra de las administraciones controlada por un partido político en sus

su historia en lo relativo al apoyo económico e infraestructuras bajo el paraguas

ha cambiado de plano como se producen estas operaciones el pez gordo se come al chico

por eso mismo yo creo que la opa de para hacerse con euskaltel ha sido la constatación del proceso de concentración en el que se mueve el sector pero también ha puesto de manifiesto los riesgos del debilitamiento de nuestra economía

económicos de este país por eso mismo lo que quiero es que nos dé tranquilidad si puede ser en relación con las repercusiones económicas en el país que contempla su gobierno en relación con la opa

legebiltzarburu andrea señor barrio si la memoria no me falla

lo votaron votó a favor de la venta de euskaltel aquí en el parlamento vasco en cualquier caso las repercusiones económicas de la adquisición de euskaltel por másmóvil

y a partir de ese momento en el nuevo escenario de las telecomunicaciones nos encontraremos ante un reto y ante una oportunidad

la operación permite ganar músculo en capacidades tecnológicas y en oportunidades de digitalización para euskadi el sector de telecomunicaciones

que posibilite empresas de mayor tamaño para competir de igual a igual con las grandes empresas norteamericanas o chinas fíjese el comisario europeo para el mercado interior el señor thierry breton

de telecomunicaciones este proceso permitirá consolidar el sector en europa

así como rentabilizar las inversiones multimillónarias necesarias para ese despliegue de las nuevas redes como referencia un dato en china

tres operadores móviles se reparten la mayor parte del mercado en estados unidos para trescientos treinta millónes cuentan con tres compañías en europa cuatrocientos cincuenta millónes de habitantes contamos con ochenta

es evidente que el mercado europeo tiene que avanzar y reforzarse si quieren ser competitivo y no perder el tren de la nueva revolución

del mercado europeo hablamos de la situación que nos afecta directamente y en este escenario la suma de euskaltel y másmóvil es una oportunidad para euskadi

gracias presidenta gracias lehendakari por su respuesta bien comparto algunas de las cuestiones que ha dicho pero sí que veo con preocupación lo que es la repercusión económica de esta operación porque me hago eco de algunas declaraciones críticas en relación con esta cuestión por ejemplo

además que fue consejero conocedor de euskaltel por dentro que yo sepa consejero o vicepresidente algún cargo tuvo

su no implicación eso es llamativo en relación con gente tan próxima

con fines además económicos estratégicos coincidentes hablaba de perjuicio económico a nivel impositivo a nivel económico a nivel de empleo y eso es preocupante que lo haga

es decir el ejecutivo estudiaba su entrada en el capital hace poco luego no se materializó es decir ahora a la vista de lo que lo que se produce en euskaltel ahora se crean sociedades para gestionar fondos lo hemos visto estos días en la prensa se amplían fondos para gestionar acciones de empresas se amplían a trescientos millónes finkatuz da la sensación de que el gobierno está

al menos aparentemente por eso pensamos en esas repercusiones económicas en esa preocupación

el sector de las nuevas tecnologías telecomunicaciones aquí estamos hablando de que hay una oportunidad interesante en relación con las bostg antes no lo existía ahora sí eso cómo lo vamos a aprovechar

sobre el gobierno tiene que dar garantías muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

en orden a lo que es la participación del gobierno vasco en el objetivo de arraigo en proyectos estratégicos con capacidad de internacionalización

muchos años también de cuál es la apuesta del gobierno vasco en todo caso másmóvil es una compañía industrial que ha garantizado que euskaltel seguirá siendo una sociedad diferenciada con marca propia con domicilio social y con residencia fiscal en euskadi

y vamos a trabajar juntos para que esta operación redunde en beneficio de los clientes y las empresas vascas vamos a dar un impulso a la estrategia

en palabras de la propia compañía másmóvil con esta operación busca dar un salto exponencial en los servicios a clientes particulares y a empresas

y por lo tanto desde mi punto de vista la unión de másmóvil y euskaltel suma desde el gobierno vasco hemos puesto los mimbres para disponer

no debemos tener miedo al futuro siempre hemos sabido responder ante los procesos de globalización y ahora también lo vamos a lograr
estoy convencido de ello señor barrio eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

el pasado tres de abril vivimos en las calles de bilbao en especial la calle licenciado poza

ausencia de distancias de seguridad entre ellas y con el paso de las horas la situación se fue agravando hasta ver contenedores quemados

disturbios y daños en muchos comercios y en la hostelería los propios hosteleros tuvieron que salir a exponerse para salvar sus enseres y proteger sus negocios la situación señor erkoreka hay que ser realistas se les fue de las manos tuvieron que tomar la decisión de detener la intervención retirar a la ertzaintza para evitar males mayores

que salieron a hacer su trabajo y desde aquí queremos reconocer su labor pero a los que se les mandó a una batalla perdida de antemano perdida de antemano

debe saber perfectamente que en este tipo de situaciones es fundamental mantener el control de la calle en todo momento está popularizada una frase del gobierno central que ustedes apoyan en madrid que dice que bueno es que esto no se podía saber y se les debe haber contagiado pero en este caso señor erkoreka

primer aviso el jueves uno de abril en lezama miles de aficionados del athletic acudieron a despedir el autobús de su equipo

en zubieta miles de aficionados de la real sociedad acudieron a despedir a su equipo

el mismo día del partido desde por la mañana comenzaron importantes aglomeraciones en el centro de bilbao lo

por eso los que pisamos la calle sabíamos que había ambiente vimos y es verdad y esto es censurable conductas personales totalmente irresponsables

prevenirlo y controlarlo claro que se podía saber todos lo sabíamos y de ustedes dependía poner los medios para que esto no se produjera

la pregunta es qué tiene previsto hacer su departamento para que esta situación no se repita muchas gracias eskerrik asko gordillo jauna erantzuteko

cargado de planteamientos sesgados parciales y fácilmente rebatibles no tendría tiempo de entrar ahora en todos los detalles no pero mire

seguro que no se le oculta que al departamento de seguridad le corresponde la superior dirección y la jefatura de la

esto significa que ni puede ni debe ni tiene intención alguna de suplantar

en lo que es el diseño y el manejo de los dispositivos y operativos policiales algo que se encomienda y llevan a cabo siempre escrupulosamente los mandos profesionales en su caso en coordinación con los cuerpos policiales de las policías locales que puedan estar coincidiendo en el asunto en este caso no estamos ante una excepción

vamos a hacer lo que siempre hace el departamento en este tipo ocasiones primero

en segundo lugar atender absolutamente a todas sus necesidades y en tercer término recordarle una vez más algo que no es imprescindible que no es necesario pero que está siempre latente en todas las actuaciones y operativos de la ertzaintza

que con arreglo a la ley han de ser respetados y deben guiar su actuación en todo tipo de situaciones dentro de los cuales destacan de manera especial el principio de proporcionalidad

como mecanismo o como garantía de eficacia en la actuación policial y en el cumplimiento de sus objetivos

eskerrik asko erkoreka jauna gordillo jauna zurea da hitza gracias señor erkoreka por su respuesta pero hombre
descargar en la ertzaintza directamente la responsabilidad usted como miembro del gobierno tiene responsabilidades verdad

en los que usted evidentemente delegue o confíe pero hombre es responsabilidad suya

poner todos los medios y todos los efectivos necesarios para que la ertzaintza no esté en situación de desprotección que es lo que daba la sensación que se producía

que va a triplicar los efectivos etcétera hombre yo lo que creo es que

erkoreka yo lo que quiero es que las cosas se hagan bien lo que quiero es que haya seguridad en las calles de bilbao confiemos

y confiemos en que entre todos logremos que no se repitan los incidentes de la otra vez yo solo le pido una cosa y le tomo la palabra por eso que ha dicho de la coordinación

pero también que si es necesario y si le faltan efectivos se coordine con la policía nacional y con la guardia civil que también tienen efectivos en euskadi y también pueden echar una mano si fuera necesario y con esto evitar que se repitan estos incidentes y que los ciudadanos de bilbao

no debe desconocer cada uno tiene su encomienda y sus funciones en segundo lugar yo he hecho una afirmación aquí en esta cámara en alguna otra ocasión haciendo una reflexión que seguramente usted comparte plenamente y es que yo no soy partidario de debatir

en torno a dispositivos operativos policiales por dos razones por una razón de eficacia porque un dispositivo desvelado es un dispositivo inutilizado

conocido evidentemente puede comprometer seriamente además la seguridad de las y los agentes

sería por tanto una irresponsabilidad por mi parte a veinticuatro horas de un evento deportivo como el que usted señala de coger aquí o expresar públicamente cuál es el contenido del operativo que está trabajado conjuntamente con las policías locales afectadas

y además sería una presunción porque insisto tratándose como se trata de operativos coordinados con otras policías que no dependen ni del gobierno vasco ni del departamento de seguridad pues sería una presunción por mi parte atribuirme todas esas funciones esa pretensión

a mí me han preguntado sobre el particular y yo lo que he dicho es que las circunstancias en esta ocasión son radicalmente distintas a las que se producían hace dos semanas y que por tanto la respuesta va a tener que ser necesariamente diferente no he hablado de rectificación he dicho que tiene que ser distinta

ahora hay un equipo vasco antes había municipios

ahora hay muchos confinados particularmente lo está bilbao y por tanto las dificultades de acceso a bilbao

la resolución y la salida tiene que ser necesariamente distinta por parte de las policías la coordinación está establecida y hago un llamamiento de nuevo reiterando algo que dijo ayer el jefe de la ertzaintza a través de los medios de comunicación por favor un llamamiento al respeto por parte del mundo de la normativa sanitaria con eso

buenos días señores y señoras

y consejeros señora tapia aquí nos encontramos una vez más y como se le decía antes al señor lehendakari ante una

al capital financiero internacional no digo especulativo porque el capital financiero es intrínsecamente especulativo le pese a quien le pese pues bien no voy a extenderme demasiado en relación a los pormenores de la operación

el señor casanova pero sí me veo obligado a recapitular y subrayar algunos aspectos de la misma para empezar ustedes se refieren a esta operación como una operación ejemplar

sí de todo lo que no se debe de hacer ejemplo de políticas agotadas

a la innovación a la tecnología todo retórica es en definitiva ejemplarizante de una deriva la de ustedes nociva para la economía vasca y para el conjunto de la ciudadanía euskadi

empresas públicas estratégicas euskadi es hoy menos soberana de lo que fue y los procesos de venta de empresas o participaciones y la privatización o externalización de servicios públicos son la razón de esta pérdida de soberanía las apelaciones al autogobierno carecen de sentido

es después mal vendido o supeditado porque no hay alternativa al juego de trileros que es el capital financiero

realmente en las últimas semanas bajo nuestra consideración se han sembrado en ciertas declaraciones señora consejera cuando

euskadi a qué se refería exactamente usted cree que a ese capital le interesa en absoluto el bienestar de la ciudadanía vasca o la posición estratégica de nuestro país en el mundo nuestra capacidad de producir de innovar o de progresar la respuesta para nuestro grupo es un claro no ya lo han recordado varias veces esta semana y hoy mismo en este pleno la formidable operación que ustedes patrocinaron

el grupo financiero icv pues bien icv se hacía con el cuarenta y uno por ciento

once millónes de euros en una acrobacia financiera solo tres años después icv vendía todas sus acciones en la salida a bolsa

valorada ya por entonces en mil doscientos millónes

un claro ejemplo del propósito de estos grupos financieros que no es más que maximizar su rentabilidad y nada más supongo que me responderá

en respuesta a la interpelación anterior que no solamente el gobierno vasco ha hecho un esfuerzo por participar a través del instituto vasco de finanzas en varias empresas estratégicas

acaba de ampliar en ciento sesenta millónes el capital finkatuz que se ha instrumentalizado a través de una nueva sociedad

que me adelante y que le responda citándole literalmente a un medio que no creo que sea sospechoso de ser afín a los partidos que conforman mi coalición un medio mayoritario en este país el ejecutivo autonómico adoptó una decisión meramente burocrática y sin trascendencia alguna con la creación de una sociedad pública que será la encargada de gestionar el fondo de toma de participaciones que hasta ahora dependían del instituto vasco de finanzas y a continuación dice todo apunta a que el anuncio de la creación

antes de las comparecencias el viernes en el pleno de control nosotros hacemos prácticamente nuestras estas mismas palabras la oposición destructiva de izquierdas no es la única que está muy disgustada con las últimas novedades y en general

de este país son varias las referencias también en prensa fruto de entrevistas

se hace una crítica clara a su política una de ellas la de alfonso basagoitia exconsejero de euskaltel que dice así a una de las preguntas que le formulan en los medios de comunicación

y dice así como en todas las cosas hay más de un modelo por un lado está el modelo de las empresas muy grandes y aunque parezca que el mundo va por ahí las cosas no son exactamente así

en un primer momento euskaltel apostó por ser una empresa muy tecnologizada

y eso es un tema importante euskaltel ha dejado de ser esa empresa medio local hicimos los pasos que había que hacer para crecer pero había que haber liderado no se lideró

cuando dicen que hay cinco años de garantía también el señor lehendakari se refería a ello

ellos saben que lo óptimo pasa después de cinco años y por lo tanto juegan a eso esto no lo décimos nosotros lo dice un exconsejero de euskaltel también como se ha mencionado antes

dice que la opa a euskaltel no es positiva para euskadi de hecho afirma así no es positiva para euskadi me da mucha pena

se pierde una empresa vasca y viene una gran empresa internacional

no tener clara cuál es su estrategia de desarrollo económico quieren emular la de los países anglosajones pero para competir en primera división

de tercera regional este paradigma anglosajón al que ustedes quieren llegar y que tanto les entusiasma

que no están suficientemente desarrollados en nuestro país y es que además de carecer de bancos con vocación

de todo lo que ha ocurrido con kutxabank pero no nos daría tiempo a entrar nos falta lo más esencial contar con una potente base científica que realice investigación de frontera el señor lehendakari también se refería a ello

qué pasos están dando en esta dirección teniendo presente que aquí tenemos una universidad pública a la que ustedes

pero con poca tradición investigadora euskadi es el territorio del estado sí que dedica mayor porcentaje

en relación a los países que hoy ocupan el liderazgo tecnológico como corea cuatro coma seis por ciento taiwán tres coma cinco alemania tres coma dos o china dos coma dos qué políticas ha desplegado del gobierno vasco en esta materia en los últimos años

han sido dos que han operado en paralelo por un lado se desmontaban

que permitían tener algo que decir respecto a ciertas decisiones estratégicas

con una absurda cantidad y diversidad de pequeños fondos de capital riesgo y otros instrumentos para impulsar abstracciones como el sistema emprendedor

y fundamentales para este país una reducción del setenta y cinco por ciento en seis años señora tapia

semipúblicas y privatizadas de forma tan chapucera como ahora está siéndolo euskaltel salieron por poner un ejemplo

un ejemplo práctico de lo que es su política en la situación actual no vale tirar del manual del perfecto gobernante neoliberal toca a arremangarse

privado hay otros modelos en los que el estado interviene sin rubor en la economía

de la unión europea observamos que alemania no duda en intervenir activamente en su industria no ignorará usted que uno de los mayores accionistas

mayor banco público de desarrollo de europa gestiona activos por valor de quinientos cuarenta y seis mil millónes pese a los condicionantes de basilea

que en fin limitan este tipo de operaciones hoy los países con modelos de desarrollo económico exitosos no se limitan a poner

continuaré en la réplica tapia andrea zurea da hitza

por otro lado señalar que está bien informarse a través de medios de comunicación recoger informaciones

saber qué se está al cabo de la calle de lo que estamos todos hablando pero no es menos cierto que resulta también importante dotarse de otras fuentes de información que a veces resultan más cualificadas que las opiniones que se pueden verter que todos vertimos en un medio

que es el arraigo de las empresas a un territorio el arraigo de las empresas a cualquier territorio en este caso hablamos de euskadi o la atracción de inversiones directas o el emprendimiento que le he creído entender que es una abstracción de verdad señor soto

cualquiera de las empresas que han nacido del emprendimiento de este país y que ha crecido porque de verdad son más que una abstracción son una realidad constatable pero en cualquier caso todos estos elementos dependen de una multitud de aspectos que los dirigentes de las empresas todas sin duda valoran a la hora de decidir si una empresa se ubica en una u otra localización

localizaciones son las más adecuadas para desarrollar una u otra actividad

lo decía el lehendakari y hago mías sus palabras y las repito el arraigo no se impone no se consigue en términos de capital o de controles públicos se trabaja

creando un ecosistema de competitividad y confort para el desarrollo empresarial

de garantizar el arraigo y en este sentido el gobierno vasco dentro de su ámbito competencial ha trabajado durante muchos años muchas legislaturas

para crear un ecosistema que sea atractivo que nos permita no solo mantener en euskadi esos proyectos empresariales de futuro proyectos estratégicos sino que además reforzando ese emprendimiento que usted

atraer inversión extranjera directa a euskadi y desarrollar nuestro tejido industrial

y desde luego con el propósito de ahondar entre otros aspectos en el empleo y en el bienestar de nuestro país todo ello lo tenemos que hacer

algunos de ellos estructurales como los derivados de las tres grandes transiciones que se han visto aceleradas como consecuencia de la pandemia

se nutre de multitud de aspectos como usted sin duda conoce aspectos que valoran las empresas cuando se van a ubicar en un lugar determinado como son los temas fiscales los temas energéticos financieros de ciencia y tecnología como usted mismo hacía referencia

formativos sociales e institucionales en cuanto a la cercanía y la colaboración público privada y todo ello marca el posicionamiento de un territorio para atraer una inversión o mantenerla activa y hacerla crecer y eso es lo que se hace y lo que se ha hecho desde euskadi lo que nos ocupa la participación directa en una empresa

instrumentos puede ser una de las vías de arraigo es cierto pero no es la única

y además debe ir acompañado de ese ecosistema porque no solo con la capacidad de actuar desde lo público se consigue el arraigo

como el que euskadi está construyendo y quiere construir a futuro en este contexto tenemos importantes empresas en euskadi lo decía también el lehendakari propiedad integra privada con origen de una inversión internacional directa que se mantienen que se refuerzan que generan empleo y que desde luego refuerzan nuestro tejido empresarial y hacen crecer a nuestras pymes y las incorporan en su cadena

no voy a dar nombres están en la mente de cualquiera de nosotros y de nosotras y no son solo inversiones recientes son inversiones de hace mucho tiempo que se mantienen durante décadas aquí en euskadi y desde el gobierno vasco trabajamos

de todos esos instrumentos de generar ese ecosistema que además de la participación a través de nuestros fondos públicos a los que no voy a dedicar más tiempo porque hemos hablado mucho de ellos pero sí me gustaría hacer referencia a algunas otras

la política clúster por ejemplo euskadi es una de las regiones pioneras como sin duda usted sabe en lo que a la política clúster se refiere

imponiendo y estableciendo en europa y donde euskadi sigue teniendo una posición relevante por su forma de actuar que ha ido modernizando y somos un actor clave a través

referente en cuanto a esta posición y que nos ayuda a actuar en esa clave nuestro tejido industrial tiene que hacer frente a todos esos retos de los que hablábamos y desde luego tenemos que aprovechar esa

y la dimensión a veces se gana a través de fusiones de absorciones no siempre vienen de fuera a absorbernos

la participación y el trabajo en cadenas de suministro donde la política clúster tiene mucho que hacer en este mundo global y competitivo

que en todos los nichos y en todas las áreas de actuación la forma de trabajar no es la misma evidente evidente y por eso desde esa política clúster tratamos de hacerlo ad hoc a cada uno de los sectores y lo hacen ellos lo hacen ellos porque son quienes están implicados con la ayuda y la colaboración del gobierno qué más

que también nos hemos dado a conocer a lo largo de este año y que requieren multitud de actuaciones que nos lleven a trabajar en aspectos de capital riesgo sí pero también en actuaciones de gestión de suelo

de gestión de instrumentos para internacionalización por cierto también recuerdo algún debate que hemos mantenido en esta cámara y algún debate que se ha mantenido públicamente donde una corporación tan relevante como la corporación mondragón en su propio seno tenía el debate

la presencia internacional la internacionalización de sus empresas la puesta en marcha de factorías de forma internacional y su impacto en la economía local ese debate también lo hemos tenido lo hemos tenido muy importante y se ha demostrado la propia corporación demostró que era relevante estar en la posición internacional por tanto

no nos damos cuenta de lo que significa arraigo hasta que hacemos un análisis muy relevante en ese sentido la red vasca de ciencia tecnología e innovación una red que

durante muchísimos años y que hoy desde luego trabajando en esos ejes que hemos establecido como prioritarios dentro del plan de ciencia tecnología e innovación

una red vasca de ciencia tecnología e innovación que en una parte además está asociada

precisamente para eso sin perder independencia de cada uno de los centros para generar capacidades críticas suficientes para hacer frente a los retos que se nos están planteando una red de centros de innovación y de centros de

el centro de fabricación avanzada aeronáutica el centro de ciberseguridad el de manufactura avanzada en energía eólica bimep el futuro energy intelligence center

y desde luego un trabajo entre empresas tractoras y proveedores que son uno de los elementos que cada vez resulta de mayor importancia como lo estamos viendo en pandemia en definitiva

deben acompañar para garantizar ese arraigo del que estábamos hablando y como usted ve

que no nacen hoy pero que mejoran se adaptan y se van

gracias señora consejera por las explicaciones que nos ha dado

de acuerdo a las explicaciones que ha dado y a todos los proyectos que están en marcha el tejido

sufrido los avatares que ha sufrido con los cierres recientes de determinadas empresas estratégicas como la que en estos momentos

que se han producido así como con la pérdida de empleo a lo largo de las últimas décadas en el ámbito industrial hemos perdido un cincuenta y cuatro por ciento

mil novecientos setenta y cinco no sé qué proceso de digitalización y de innovación se ha hecho para afrontar esa pérdida permanente de tejido productivo y de empleo asociado al mismo en cualquier caso que sí que el modelo de los clúster desde luego ha sido y fue un acierto sin duda hay que reconocérselo pero lo que para nosotros no es sin ninguna duda un acierto es lo que ustedes denominan generar el ecosistema necesario para que determinados fondos de inversión internacional aterricen como si esto fuese una pista de aterrizaje en euskadi para maximizar sus beneficios al entrar en el capital de determinadas empresas y le digo que no nos parece el modelo

sí a lo fiscal y ya hemos tenido el debate de esta cuestión en más de una ocasión a disponer de una competitividad fiscal porque además así se denomina en ese

para que los territorios históricos de euskadi tengan en términos fiscales mayor competitividad con respecto al resto del territorio del estado siendo

la segunda en los rankings de competitividad fiscal por detrás de madrid quiero decir que me parece que esta reivindicación de este modelo

sin duda y el del fomento y la participación pública en las empresas estratégicas del país

en fin un exconsejero de euskaltel y el presidente de la cámara

no creo que sean elementos menores a la hora de ponerlos encima de la mesa cuando critican la operación

por ciento de participación del gobierno vasco cantidad muy importante

y hombre sí después de la venta de las cajas de ahorros de su participación y del gobierno vasco pues hemos perdido la capacidad de intervenir en la actividad y en la dirección que euskaltel debiese haber tomado pero como con euskaltel con otras tantas empresas aquí ha habido un progresivo proceso de descapitalización

en determinadas empresas estratégicas y eludir eso para ponernos encima de la mesa los proyectos que se están llevando a cabo ahora para esa digitalización y ese proceso de innovación en el país pues es eludir una parte que para nosotros es prioritaria y que debería haberlo sido en la consecución del proyecto de desarrollo económico

del país y hablaba también en ese ecosistema que hay que generar de la investigación y el desarrollo yo se lo he mencionado en mi primera intervención

que es fundamental más allá del fiscal de la política y de la estructura fiscal

y ahí creemos y usted además nos lo ha verbalizado así en alguna comisión

nada con respecto a la investigación y el desarrollo en su caso que haya una colaboración público privada en la que lo privado sea quien lidere

creemos que bien habrá que colaborar con el sector privado pero que en ningún caso

los objetivos en investigación y desarrollo que el gobierno vasco

potenciarse en cualquier caso creemos que

hacia donde vamos encaminados con esos ecosistemas que pretenden generar de incentivos fiscales no benefician a la ciudadanía y lo que hacen es destruir progresivamente

señor soto cuando he descrito el ecosistema existente en euskadi me faltaba una palanca relevante a la que sí quiero hacer referencia porque además está aquí el consejero yo creo que la parte de talento la cualificación de nuestras personas merece una especial atención y creo que se está haciendo un esfuerzo muy relevante

pequeños las más pequeñas de nuestras casas tratando de prepararlos para ese futuro que ya está aquí en el ámbito universitario contamos con cuatro universidades que desde luego están

y en número de presencias sino creciendo desde el punto de vista de su posicionamiento en cuanto a educación y de su posicionamiento en cuanto

y un ámbito de formación profesional como el ejemplo vasco que es ejemplo desde luego a nivel europeo y que también lo tenemos que reconocer parte de ese ecosistema

solo uno de los componentes del ecosistema al que no he hecho más que referencia puesto que también trabajamos con las administraciones

pero en lo que depende del gobierno vasco desde luego creo que he hecho una referencia de lo que supone el ecosistema vasco que desde luego no es garantía cien por ciento de que no existan dificultades por supuesto

desde luego absolutamente enmarcados dentro de un ámbito global todo lo que ocurre en el mundo más lejano y más cercano nos afecta y por tanto lo que tenemos que hacer es tratar de que

de nuestra empresa y desde luego no es eludir nuestra responsabilidad es tratar de colaborar para crecer para responder a lo que necesitamos y hablaba de pérdida de empleo industrial hemos perdido empleo industrial en lo que se conocía

más tradicional pero sin embargo hemos crecido en otro tipo de empleo

mucho más ubicado desde el punto de vista estadístico en el ámbito de servicios pero todo lo que son desde luego

y todas las tecnologías de comunicación de información y comunicación por cierto de la que estábamos hablando y que van a ser no solo necesarias sino imprescindibles para el desarrollo de futuro y no solo desde el punto de vista de digitalización también para el ámbito energético y el ámbito de la crisis climática han de ser ubicados en este momento como empleo

y desde luego cuando hablamos de ecosistema para atraer inversiones creo que no estamos haciendo referencia desde luego como gobierno a la atracción de fondos de determinadas características estamos hablando de atracción de inversiones muy recientes por ejemplo del ámbito salud como ha sido

y que desde luego ha sido fruto de esa atracción y de que han valorado correctamente creemos desde luego desde el punto de vista del gobierno vasco lo que supone el ecosistema para ellos o lo que fue progenika en su momento que también nace

muy relevante en esta pandemia que estamos sufriendo y desde luego lo va a ser en el futuro pero

en las opiniones que emitimos pero también le digo que es importante atender a otro tipo de información y le pondría un ejemplo y es el caso vasco que se estudia en harvard desde hace bastantes años y no se estudia porque

el modelo interplanetario sino porque tiene una serie de características diferentes por nuestra forma de actuar y porque somos un país pequeño bueno lo estudia porter de la mano de porter creo que bueno nos conoce bastante bien y se estudia

a eso hago referencia y desde luego para terminar hablaba usted

ahora bien el plan de ciencia tecnología e innovación aprobado en el consejo

y contribuir a financiarlo contribuir digo porque la financiación máxima tiene que ser de liderazgo privado el privado tiene que implicarse para que realmente obtenga los resultados que necesita para ser competitivo en el mundo

no debemos liderar lo que deben investigar las empresas pero sí establecer cuáles son las líneas prioritarias y creo que el pcti lo recoge perfectamente eskerrik asko

onartu den legeak dena geldiarazi du ahora bien es una buena noticia que usted desista por fin pero yo creo que debiera dar

sobre el dinero que se ha enterrado en este proyecto sin sentido porque han sido millónes de euros despilfarrados y creo que su gestión también queda tocada con este fiasco

al hilo de euskaltel en una entrevista usted hacía unas declaraciones a mí me dejaron frío o así se recogieron al menos lo que decía usted nuestro papel el del gobierno es el de iniciar nuevos sectores no vivimos en un país comunista

no ha de ser el propietario hidrocarburos de euskadi señora tapia es pública al cien por ciento qué pasa que para los combustibles fósiles usted si es comunista o cuál es la historia o usted es ultraliberal con lo rentable y comunista

difamar a lo que es común señora tapia socializando treinta y siete años de pérdida de hidrocarburos de euskadi que siguen aumentándose las pérdidas

que tenía una buena oportunidad de anunciar el fin del empeño perforador antes de que se le cerrasen las puertas no lo hizo

le ha pasado por encima hoy creo que tiene una buena oportunidad de anunciar que van a iniciar el procedimiento de cierre de hidrocarburos de euskadi

es dinero que nos ahorramos para poder invertir en la buena dirección yo creo que se tiene que dar

pero no vamos a esconder la realidad allá donde participa no participa al cien por ciento

actuaciones que lleva adelante siempre actúa de la mano de uno o más privados con los cuales tenemos una serie de responsabilidades que son importantes

y siempre actuamos en minoría y lo mismo ocurre en aquellas intervenciones no solamente

en exploración y explotación de hidrocarburos en aquellas otras empresas en las que participa el ente vasco de la energía que es cien por ciento público pero no participa al cien por ciento por tanto

cuando hablamos del tema del gas insisto en la propia ley se utiliza se habla del año dos mil cuarenta y dos como aquel año en el que la utilización del gas la exploración y explotación ya existentes y cuyas actuaciones en este momento no se ponen desde luego en riesgo en el conjunto del estado entiendo

y entiendo que en el mundo va a ocurrir algo similar porque va a seguir siendo una energía de transición y le decía y le reitero es importante que nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a dejar de

contamina la atmósfera del mundo exactamente igual que si se hiciera en euskadi vamos a trabajar y nuestra voluntad es esa para que si realmente creemos en que la energía renovable va a ser

vamos a trabajar conjuntamente porque sea una realidad gas aquí no pero en otros lugares también el mínimo eskerrik asko tapia andrea

movilizaciones madrugones sacrificios de tiempo y dinero dudas y convicciones aunque habían pensado creo que no hay nada más político que esa actitud porque mirar de cara

es una de las respuestas más políticas que podemos encontrar en una sociedad en la que algunos nos quieren imponer la filosofía del sálvese quien pueda una empresa como tubacex que trabaja en un sector que es cíclico hay años en los que tienen muchas ganancias y otros en los que tiene

a eso pero no se puede responder a una situación generada por la crisis del covid con despidos y destrucción de empleo y un gobierno que dice preocuparse por un empleo decente y por una política industrial seria no puede responder a una

y la acción policial por eso señora tapia qué van a hacer para defender el empleo en tubacex eskerrik asko blanco andrea erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

hay un tema con el que estábamos hablando con el señor otero la situación del oil gas no es coyuntural no es solo fruto de la pandemia

que no van a verse recuperadas y creo que tenemos que ser conscientes de la necesidad de diversificación y de buscar un salto hacia el futuro que es en lo que estamos trabajando desde

blanco andrea zurea da hitza no podemos pasar por alto a la hora de hablar de la respuesta del gobierno a esta
conflictividad laboral bueno pues una crítica también a la actitud de la ertzaintza una actitud que más allá de la defensa de sus obligaciones se ha visto salpicada en muchas ocasiones

cómo han dificultado en muchas ocasiones la entrada de los propios representantes sindicales a las mesas de negociación

señora tapia se nos muere tubacex es una de las empresas tractoras de la comarca a eso hay que añadir el cierre de valvospain hace bien poco con otras ocho ochenta personas despedidas a eso hay que añadir más de

autónomos transportistas que también se van a ver afectadas más el pequeño comercio y la hostelería que también se verán afectadas pero que ya vienen heridos y heridas de atrás

baizik eta langileen kontura dirua aurrezteko borondatetik ayer se empezaron a materializar los noventa y cinco despidos tragedias con nombres y apellidos pero no quiero hacer demagogia porque sabemos que en manos del gobierno tampoco está salvar ni a cada empresa ni a cada puesto de trabajo

la razón nosotras en cambio creemos que se puede hacer más sobre todo si quieren llegar a su objetivo de bajar la tasa del desempleo a menos del diez por ciento porque en aiaraldea lo van a tener difícil estamos por encima del quince

de control podían haber puesto en práctica medidas correctoras porque los análisis además creo que es conveniente hacerlos para eso creemos que podían haber hecho más lo difícil en su caso sería hacer menos porque la política industrial no consiste en hacer de notario de los problemas quienes sí lo están dando todo

despedir para ellos y para ellas todo nuestro reconocimiento y apoyo porque en tubacex no sobra nadie eskerrik asko blanco andrea

señora blanco estamos de acuerdo son situaciones dramáticas y en ningún caso hemos justificado la situación hemos hablado de que es necesario un acuerdo y hemos hecho un llamamiento a ambas partes ahora bien

en ayala además de trabajar en esa ponencia de trabajar con los alcaldes de trabajar con todos los implicados en lo que estamos creo que ustedes y nosotros y toda la cámara tenemos que pensar en el largo plazo en el medio y largo plazo es decir hacia qué tipo de empresas puede diversificar hacia qué tipo de actuaciones y para eso hemos puesto en marcha

y que tienen que diversificar y trabajar quizá por ejemplo en el sector del hidrógeno donde ya están haciendo esfuerzos importantes trabajar con la formación profesional dual para que esas personas tengan la formación que requieren acorde a

y las posiciones que van a tener en el futuro trabajar de acuerdo con lo que se ha acordado en la mesa de diálogo social para que lanbide también recualifique a esas personas que ya se encuentran

en desempleo o en una situación de modificación de actividad tal como se ha planteado en estos momentos y que seamos capaces a través de esa estrategia vasca de empleo que se presentó

de tener un empleo de calidad pero sobre todo un empleo de futuro y en este caso creo que nos estamos jugando no solo aiaraldea sino todo un sector de empresas asociadas a un ámbito que está en plena transición en plena transformación desde luego tenemos que tomar las decisiones adecuadas tanto desde el ámbito empresarial como desde el ámbito del gobierno y por supuesto del ámbito de los trabajadores y trabajadoras

ya no es un problema coyuntural de pandemia es un problema al que la pandemia ha llevado a acelerar su situación complicada ya veníamos en una situación crítica
y la pandemia lo ha acelerado tenemos que transformar este tipo de actuaciones y en ello nos tenemos que poner eskerrik asko eskerrik asko

supongo que estaremos de acuerdo en que la inteligencia artificial se está configurando como uno de los ejes de competitividad global más potentes actualmente

supone un cambio radical en las reglas del juego y se está convirtiendo cada vez más en un factor estratégico en las relaciones internacionales y en la geopolítica la carrera

sino simplemente por no quedarse fuera de juego está ya muy avanzada

y es muy agresiva estados unidos y china como todos sabemos

países como canadá estados reino unido perdón israel corea china por ejemplo ha anunciado que para dos mil treinta quiere ser el país líder en inteligencia artificial tanto en teoría de investigación como en tecnología y aplicaciones y para ello ha anunciado la inversión de nada más y nada menos que de ciento veinticinco mil millónes de euros no es de extrañar que sea uno de los países que más talento

está captando a nivel internacional sobre todo talento con experiencia

canadá y francia más cerca de nosotros en europa tienen ambiciones estratégicas y están realizando importantes inversiones para convertirse también en polos globales

aspectos siguiendo una estrategia de nicho la india por ejemplo quiere convertirse en un garaje

especializado en probar aplicaciones específicas la estrategia de australia se centra en la adopción sectorial de la inteligencia artificial mientras que canadá lo hace

por eso hoy le pregunto directamente señora consejera qué estrategia o qué actuaciones concretas está llevando actualmente a cabo su consejería para colocar a euskadi

más relevantes para transformar nuestra economía y desde ese punto de vista sin duda conoce que el día treinta del pasado marzo aprobamos en consejo de gobierno la estrategia de transformación digital dos mil veinticinco que ha sido remitida a esta cámara una de las palancas principales de actuación precisamente es la inteligencia artificial que va a guiar una serie de actuaciones que se desarrollan en todos y cada uno de los departamentos aquellos dirigidos

creo que lo he comentado en esta cámara una aplicación muy relevante en cuanto a traducción de castellano euskera euskera castellano basado en inteligencia artificial y que desde luego es

existentes por tanto también la administración lo está utilizando pero necesitamos además poderlo utilizar en todos los sectores de la vida social y de la vida

de euros pero la inteligencia artificial además va a ser desarrollada en la parte que me corresponde como departamento

que es un centro vamos a decir en red un centro sin sede propia

a través de un grupo promotor se pone en marcha y trabaja una estrategia muy no sé si voy a decir de nicho pero muy aplicada a las necesidades de nuestro entorno empresarial

yo no quería hablar de la estrategia de transformación digital precisamente para no salirnos del tema pero vamos es que en esa estrategia que sí que me ha dado tiempo a leer y que además tendrá supongo que sus repercusiones parlamentarias correspondientes

y sí que he buscado con interés a ver si encontrábamos allí más chica porque sí que lo estaba buscando pero vamos no lo he encontrado en fin

que no estamos diciendo que no se esté haciendo nada claro que están haciendo cosas

pero en este tema creo que no debemos ser ni conformistas ni tener autosatisfacción

es verdaderamente muy reñida no debería usted entiendo yo ampararse en los esfuerzos que están realizando otros agentes

y supongo que estaremos de acuerdo supongo que compartirá conmigo que necesitamos crear las condiciones para convertir a euskadi en un referente internacional en inteligencia artificial es decir no se trata de hacer algo se trata de convertir a euskadi en un referente internacional en inteligencia artificial de forma que se constituya en una alternativa real

que euskadi tiene hasta ahora y que están en proceso de declive algunas de ellas por eso le pregunto no si estamos haciendo algo sino si el gobierno vasco dispone de un plan potente

es decir no que la señora consejera que su departamento debería tomarse este tema mucho más en serio hacer inversiones mucho más potentes y aprovechar la oportunidad de convertir en inteligencia artificial en un referente a nivel mundial

está trabajando en algunos ámbitos de actuación pero no nos parecen suficientes se podrían hacer muchas más cosas por ejemplo se podría crear un parque empresarial especializado sobre este tema con infraestructuras adecuadas se podrían poner en marcha medidas fiscales incentivadoras de la inversión en inteligencia artificial

eskerrik asko presidente andrea señor gil dispuesta a atenderle en cualquier momento y a que hablemos de todos estos aspectos desde luego lo que estamos pretendiendo hacer a través

es crear un grupo promotor importante de aquellos agentes que ya son internacionalmente reconocidos para que ayudemos a poner en marcha una estrategia que entre sus líneas de actuación

es la de primero identificar cuáles son las capacidades que tenemos en estos momentos y cómo podemos hacerlas crecer y tenemos

promocionar desarrollar retener y atraer talento que va a ser imprescindible y en este momento no tenemos suficiente conectar y proyectar a las empresas con redes internacionales para

fomentar nuevas empresas en el ámbito de la inteligencia artificial es decir el emprendimiento también tiene que actuar en este sentido tenemos algunas empresas muy muy relevantes en emprendimiento por ejemplo que utilizan la inteligencia artificial y que son internacionalmente conocidas como es sherpa por ejemplo o una empresa como bunt planet que en este momento utiliza la inteligencia artificial para gestionar el agua

menos pérdidas tenemos empresas de inteligencia artificial en temas médicos que también son relevantes luego aprovechemos esas capacidades y hagámoslas crecer siempre en esos ámbitos que le decía al señor soto que hemos establecido que sean prioritarios en euskadi que es donde tenemos capacidad

de todo el territorio de euskadi y generemos trabajo futuro

abordar nuevas áreas además de estas establecidas en el pcti esas son las líneas de actuación en las que estamos trabajando con ese grupo promotor del que le hablaba es verdad con centros tecnológicos centros de investigación referentes en esa área y con empresas que ya están trabajando y que tienen un recorrido para qué

de ese conocimiento y estar bien conectados también internacionalmente porque creo que es uno de los elementos más importantes como usted decía con ámbitos como quebec en canadá con ámbitos con ámbitos en el sur de corea donde por cierto algunas de nuestras empresas también están allí trabajando es decir constituir también una red internacional de la que empecemos a formar parte y tengamos esa vocación que usted decía de liderazgo creo que todavía no estamos en esa posición pero tenemos que caminar
hacia ella por tanto bueno le agradezco su disposición y me gustaría poderlo hablar más en profundidad muchísimas gracias eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako

soto jauna zurea da hitza señora consejera como usted decía

cada día más una realidad el cambio de modalidad del transporte por carretera hace que en no mucho tiempo los motores eléctricos

con motores de combustión así como se dará la necesaria transformación en otros sectores por tanto a la vista de la situación

está en plena transformación pero no porque el gobierno lo lidere o lo deje de liderar sino porque ellos están en el mercado y saben cuáles son sus necesidades ahora bien

se hace desde cada una de las empresas pero también en el clúster y donde actuamos decididamente después tendremos ocasión de hablarlo eskerrik asko tapia andrea

años millónes y millónes de euros a día de hoy también hay toda una infraestructura

y privado en torno a la obtención de combustibles fósiles pero este no es como usted bien sabe el único uso que se le puede dar al petróleo como materia

no se ha explotado en toda su capacidad para obtener polímeros de todo tipo

la combustión para la obtención de energía no vamos a incidir en ello ahora porque tampoco habría tiempo para tratarlo pero sí me gustaría poner encima de la mesa lo que hoy mismo también se evidenciaba

este proceso de transformación del sector también requiere de una adaptación en relación con el empleo y aquí creemos que efectivamente el gobierno vasco acompaña participa como usted bien dice pero no lidera

la actual transformación del sector también va a venir ligada como usted bien decía antes a una necesaria transformación y recolocación de buena parte de las personas que trabajan en dicho ámbito y aquí es donde nosotros

una falta de liderazgo por parte del gobierno vasco la previsión del cambio en el sector

y el gobierno vasco no ha liderado el proceso de cambio en lo que se refiere a la transformación en el empleo no podemos encontrarnos con situaciones como las que hemos vivido

la realidad y la previsión debiese de haberse dado con antelación

estamos en una situación lo suficientemente dramática en muchos casos como para que a día de hoy estemos en un proceso de inicio de la reconversión

del empleo por tanto creemos que no puede este sector

tiene que hacer y liderar una transformación planificada y sobre todo en lo que se refiere a la cualificación y a la adaptación del empleo

no se quede en la calle sin opciones de futuro eskerrik asko eskerrik asko soto jauna tapia andrea zurea da hitza

gobierno vasco con el sector en primer lugar en el año dos mil diez ya constituimos una sociedad que no era cien por ciento pública a través del eve denominada

para electrificar la movilidad luego ya estábamos hablando ya en el dos mil diez de

hacia un vehículo eléctrico y hacía las unidades de recarga de ese vehículo eléctrico que son críticas para su futuro en segundo lugar toda la colaboración con el resto de administraciones en este caso la diputación foral de bizkaia para atender a esa diversificación a la que hacíamos referencia antes

intelligence center es decir cómo vamos a hacer transitar

ese tejido todas esas empresas hacia por ejemplo dejar de ser fabricantes de todo tipo de elementos necesarios en el proceso de gasificación o de refino de petróleo para un hidrógeno verde cómo lo vamos a hacer a través de qué medidas con qué tipos de acompañamiento y en qué sentido eso también está en marcha y desde luego ecosistemas con itinerarios y programas que faciliten ese cambio a través de la formación tanto y lo decía antes universitaria formación profesional pero también a través de ese compromiso en la mesa de diálogo social

versátiles en multitud de empleos dentro de la empresa o que puedan modificar y cambiar de empleo a través de esa recualificación desde luego

desde hace mucho tiempo no son nuevos pero este tipo de modificaciones en un tejido productivo como ha sido tan relevante como el petróleo el del refino o el del gas requieren tiempo

y desde luego uno de los elementos que hemos puesto en marcha en este momento es precisamente un programa especial para diversificación

sino de esas proveedoras más pequeñas que son imprescindibles para que se haga realidad esa transformación dotado este año de once millónes de euros para precisamente diversificar y transformarse creo que es el camino que tenemos que adoptar ayudando a todo ese sector y hay algo en lo que me va a permitir discrepar un poco

para poner en marcha diferentes tipos de polímeros a través de la industria electroquímica la apuesta que hemos hecho

es poner un especial énfasis precisamente en la bioeconomía es decir todo el tipo de materiales y todo el tipo de actuaciones

todo lo que es forestal bioeconomía forestal pero no la única de verdad de transformar ese sector de ir evitando poco a poco

ni para la otra y hacer la transformación hacia nuevos materiales basados en esa bioeconomía esa es la forma de trabajar y en lo que estamos en estos momentos eskerrik asko

mi postura acerca de modificar el sistema tributario en estos momentos eta nire jarrera da bai jaurlaritza eta foru aldundiak

eta pandemia aurreko mailetan kokatuko gaituzten hazkunde datuak eman arte desde la aprobación del presupuesto en febrero hemos emitido también como sabe

que ha tenido una gran acogida en los mercados esto quiere decir que el gobierno vasco cuenta con la confianza de los inversores

ciudadanía en estos momentos creo que todos y todas nosotros es certidumbre claro es que ahora ya no se puede modificar a golpe de timón o por una coyuntura muy concreta que más pronto o más tarde

sabe usted que las previsiones económicas del gobierno vasco contemplan un crecimiento del seis coma siete por ciento para dos mil veintiuno y del cinco coma siete para el dos mil veintidós

cómo van a ser los impuestos del futuro en este sentido tanto el gobierno como las diputaciones forales estamos inmersos en un proceso de reflexión y análisis

y también de retos de futuro a los que todas las instituciones de este país nos enfrentamos

a los cambios fiscales que procedan pero ahora mismo no toca eskerrik asko eskerrik asko

mientras el producto interior bruto ha sufrido una caída importante de manera global y en el caso de la comunidad autónoma vasca de un nueve coma cinco por ciento aproximadamente el top ten de forbes

ha pasado a tener cero coma noventa y seis millónes de euros que viva el mal que viva el capital como decía un compañero de bancada esta misma semana y esta tendencia es estructural

se saquen la billetera y apoquinen para por ejemplo fortalecer unos servicios públicos cada vez más mermados y así poder equilibrar un poquito

zergak ukitzeaz ahora no toca por qué no toca y no me venga con la excusa que ya la ha sacado sempiterna de la evaluación de su última reforma fiscal de la mano del partido popular bi

desde luego se refiere también a otras cuestiones a las que usted no ha hecho referencia y le voy a citar solo cinco primero apoyar la recuperación económica y el empleo

un plan de empleo en el gobierno además el plan de apoyo a las zonas altamente vulnerables hemos aumentado la inversión pública en novecientos cincuenta y cinco millónes este año hasta los novecientos cincuenta y cinco perdón

segundo mayor esfuerzo de gasto público un presupuesto que se ha incrementado en setecientos setenta millónes de euros ayudas directas a empresas

a través de los departamentos es decir no hay recortes apoyo a hogares y familias ya conoce usted los programas

de la vivienda y de la conciliación créditos

y podría seguir pero voy a terminar con lo que he empezado señor estarrona ahora no toca subir los impuestos es cierto

progresivo pero eso lo aplicaremos en el sistema fiscal que vamos a implantar

con mayor capacidad de apalancamiento mayor efecto multiplicador sobre el conjunto de la economía a corto y medio plazo le quiero avanzar en una cuestión

del estado en el caso de salud por ejemplo ha sido el noventa y nueve por ciento y educación un cien por ciento el gobierno gasta

el empleo perdido y el gobierno está en ello eskerrik asko

honako hau jasotzen du hitzez hitz los servicios públicos de salud en el ámbito de sus respectivas competencias aplicarán las medidas precisas para garantizar el derecho a la prestación de ayuda para morir en los supuestos y con los requisitos establecidos en esta ley beraz

egitearen aurka dauden osasun profesionalenak la ley de eutanasia era un instrumento legal demandado por la gran mayoría de la sociedad

nos obliga a asumir una serie de actuaciones que garanticen su cumplimiento la primera la creación de la comisión de garantía y evaluación que supone

y de los comités de ética de intervención social de las diputaciones forales la publicación del decreto organizativo de creación de la comisión y de la orden de la consejera de salud designando nominalmente a sus miembros reunión de constitución y propuesta de reglamento de orden interno

de orden interno el resto de actuaciones necesarias para poder garantizar el cumplimiento de la ley con todas las garantías tanto para las personas solicitantes como para los y las profesionales que deben prestar el servicio son las siguientes

sí publicación de la ley y del informe sobre la eutanasia de la comisión

y del departamento de salud la publicación además debe ser pedagógica para la ciudadanía y contener también las respuestas a las preguntas más frecuentes publicación en la intranet de osakidetza de la ley y de las explicaciones pertinentes desde los puntos de vista

y jurídico presentación de la ley y de las acciones de desarrollo y las organizaciones sanitarias de osakidetza con el apoyo de los comités de ética asistencial

así como entre los centros sanitarios privados concertados o no

también se prevé la creación del registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia al realizar la ayuda a morir como he explicado

tanto los derechos de las personas que quieren ser asistidas en este proceso como los derechos de las personas profesionales que no desean participar en el

el diseño del documento de declaración de la objeción de conciencia el diseño del propio registro que debe contemplar su ubicación custodia accesos mantenimiento etcétera desde el punto de vista de la tramitación administrativa hay que diseñar y publicar los documentos oficiales de los procedimientos contemplados en la ley

médica para morir denegación de la prestación de la ayuda médica para morir consentimiento informado

documento de puesta en conocimiento de la presidencia de la comisión de garantía y evaluación por parte del personal médico responsable

documentos primero y segundo de comunicación a la comisión de garantía y evaluación

hay otras derivadas de la aplicación de la ley como son los cambios en la historia clínica electrónica

la labor del personal médico responsable y consultor así como de la propia comisión que se hace preciso crear en osabide

etcétera y finalmente la creación del registro oficial de eutanasia este registro no debe realizarse en el plazo de entrada en vigor de la ley ya que no obliga la misma a crear es la intención del departamento de salud abordar su creación

todo esto está diseñado y la ruta está establecida con un grupo de trabajo específico que lleva abordando esta tarea

aprobación de la ley desde el mismo momento de la aprobación de la ley

personal del departamento de salud y de osakidetza y de hecho ya está firmada la orden de creación de la comisión

que está establecida en la comisión de garantía y evaluación estamos en marcha para dar cumplimiento a esa ley

puedan hacerlo debidamente acompañadas por personales de nuestro servicio de salud eskerrik asko eskerrik asko sagardui andrea

behar ditu sin duda el escenario actual es complicado

con una transmisión del virus absolutamente disparada con una tasa de incidencia acumulada

bilbao y vitoria capitales de provincia con la peor tasa de incidencia de espalda

saturadas ciento treinta pacientes como nos recordaba hoy el lehendakari con nuevas variantes aparte de la británica que tiene

contagios ocasionados por la variante nigeriana sin duda también se han trastocado los planes de vacunación con lo que ha sucedido en relación a la vacuna astrazeneca

aparte de los cambios criterios en relación a la edad de vacunación de la vacuna

también se ha generado una gran incertidumbre como es lógico entre aquellas personas que se han inyectado una primera dosis y que obviamente pues están a la espera bueno por saber

para este colectivo de personas que ya han sido vacunadas con la primera dosis de astrazeneca aparte se ha generado una gran incertidumbre

de mayo y desde el partido popular hemos

desde hace un año desde que estamos inmersos en esta situación para que precisamente no hubiera que

a decretar un estado de alarma que además necesita la aprobación del congreso de los diputados

no la primera vez pero si las sucesivas una aprobación y obviamente

el estado de alarma correspondiente sino que es necesario que tengan un paraguas normativo que les dé seguridad jurídica para adoptar aquellas medidas

a la pandemia tenemos que recordar que durante todo este año la respuesta del ejecutivo del partido socialista y de podemos apoyada por el partido nacionalista vasco digo apoyada porque es un

sostenido y apoyado en el partido nacionalista vasco ha sido la inoperancia y la inacción absoluta en este tema frente a la insistencia del partido popular nosotros además

y hoy me he alegrado de escucharle al lehendakari esta mañana hablar de modificaciones en esta ley concreta en la ley de medidas especiales de salud pública porque durante todo este año

como el señor urkullu en el gobierno de españa no le he oído nada en relación a las modificaciones que había que realizar en la legislación

a las propuestas del partido popular que han sido reiteradas e insistentes en esta

claro tenemos un lehendakari que pasó de calificar el estado de alarma como un ciento cincuenta y cinco encubierto ahora a ser su máximo defensor

la lectura también que nos o a la conclusión que nos lleva toda esta situación es que la pandemia

de cuál es la cruda realidad y dónde están sin duda las prioridades de los ciudadanos

pesar de ser una de las comunidades autónomas con las restricciones más severas tengamos unos de los índices más altos de contagio la situación nos decía el lehendakari también esta mañana que es mala pero bueno sin duda nosotros creemos

que hay capitales de provincia como vitoria y como bilbao que están a la cabeza de los contagios en el ranking de todas las ciudades las capitales de provincia de españa yo creo que no es aceptable que se diga como ha dicho el lehendakari también esta mañana aquí o creo que no es comprensible

las cifras no son las cifras que tenemos en estos momentos por lo tanto creo que urge una reflexión

y nosotros vamos a poner encima de la mesa una serie de cuestiones que creemos que son relevantes en las que hay que hacer hincapié en estos momentos creemos como se lo dije el otro día señora consejera en la comisión no se ha hecho un verdadero análisis epidemiológico sobre las causas de los contagios y los brotes

decisiones pero no sabemos qué porcentaje de contagios se produce en el ámbito familiar en el entorno familiar en el ámbito de la hostelería

es fundamental para poder atinar en las medidas que hay que poner en marcha aquellas medidas que son necesarias para atajar la pandemia

la capacidad de anticipación y de prevención es absolutamente esencial

cumplir las medidas a los ciudadanos pero el gobierno tiene que anticiparse también

no entendemos cómo se pudieron permitir las concentraciones masivas previas a la final de la copa del rey en bilbao y en san sebastián

que se iban a producir iban a suponer un alto grado de transmisión del virus es que eso se sabía por lo tanto el gobierno tenía que haber previsto y haber impedido que se produjeran concentraciones masivas que además produjeron altercados públicos que supusieron un claro riesgo

en los contagios que se están incrementando por qué se ha sido es la pregunta que nos estamos haciendo muchos ciudadanos por qué se ha sido tan restrictivos

yo no digo que se tengan que tomar pero el gobierno vasco lo que está claro es que no las ha justificado debidamente porque no sabemos dónde se producen los contagios en euskadi no tenemos ese mapa de contagios y de transmisión

como decía ahora con las concentraciones que se han producido con las finales de la copa del rey creo señora consejera que también falta pedagogía cuáles son las medidas explicarlas bien cuáles son las más importantes saber si se entienden

que estamos un poco atónitos cuando vemos concentraciones en determinados ámbitos en el transporte público en los comercios determinados ámbitos de la calle

se pueda salvaguardar un cierto orden el cumplimiento de las medidas y eso sí es obligación de los diferentes gobiernos y de las diferentes administraciones cada una con competencias en la materia

para detener las cadenas de transmisión del virus no conocemos el origen de los contagios esa cadena de posibles contagios ya le decía el otro día usted me decía que no pero los medios de comunicación han seguido con lo mismo que el índice de trazabilidad

no existe un plan de vacunación con los grupos a priorizar y los colectivos insertos en cada grupo qué pasa con los enfermos de alto riesgo señora consejera que no están actualmente en el radar de osakidetza enfermos crónicos no están en el radar de osakidetza porque nos lo están diciendo todos los días

a la hora de vacunarse por eso le formulamos esta interpelación si está en disposición de corregir aspectos concretos

aclarar las dudas que persisten generar confianza dar mensajes claros y entendibles y sobre todo coherencia coherencia en las medidas y
sobretodo corregir estas deficiencias que muchas de ellas he puesto encima de la mesa eskerrik asko garrido andrea sagardui andrea zurea da hitza

hay una cosa que ha dicho en la que sí coincidimos que las comunidades autónomas debemos de contar con herramientas jurídicas que nos garanticen

inmediata y con garantías me alegra oírle decir eso que las comunidades autónomas debemos de contar con herramientas suficientes

interpelación plantea tres cuestiones los aspectos que permitan detener la alta propagación de la covid la trazabilidad

y la vacunación de colectivos vulnerables yo sobre todo este tercer aspecto creo que ya le había quedado suficientemente claro en la intervención

pero no entonces como les dije lo mismo que no me voy a cansar de repetir cuáles son las medidas preventivas que tenemos establecidas de repetir

nos planteemos la responsabilidad que tenemos ante la propagación de esta pandemia voy a volver a responderle al respecto

ya saben ustedes muy bien cuáles son las medidas aplicadas en euskadi para contener la pandemia son

y países del entorno las mismas que han tomado esas comunidades y esos países adaptándolas eso sí en cada caso

de euskadi y la propagación de la covid voy a volver a recordar las más importantes cierre perimetral de euskadi cierres perimetrales municipales y territoriales cuando la tasa de incidencia acumulada de casos

cierre parcial del interior de establecimientos hosteleros con limitación de actividad también deportiva y por supuesto además las medidas personales el uso correcto y continuo de la mascarilla y mantener la distancia física

especialmente en espacios cerrados evitar al máximo la interacción social entre personas no convivientes

incluidos los domicilios maximizar la ventilación de los espacios cerrados y por supuesto el lavado frecuente de manos

lo que corregirá la evolución de la pandemia usted misma además lo admitía en la comisión de salud son medidas rigurosas

el trabajo de rastreo desde su implantación los equipos de rastreo han tenido dos objetivos el primero de ellos prioritario

a través de contactos directos de personas que han desarrollado la enfermedad o han resultado positivas ante una

a otras personas infectadas para aislarlas cuanto antes y seguir evitando la propagación aquí se incluyen los contactos directos y convivientes

de detección esas son las personas que incluimos

que se aporta al ministerio y eso significa por encima del cincuenta por ciento de todos los casos positivos de euskadi por encima por ciento antes antes de que sean conscientes de que están sufriendo

contagio hay un segundo objetivo en la red de rastreo

para saber si hay coincidencias con otros positivos eso nos ofrece la información sobre

y facilitamos información al respecto este es el aspecto que no se incluye en los datos facilitados

a la hora de hablar de trazabilidad y los equipos de rastreo están además al día en sus tareas todos los casos positivos de cada uno de los días son rastreados en el día hoy en euskadi con más de setecientos profesionales destinados a ello y también aplicamos el retrorrastreo

información que de la información parlamentaria con respecto al tercer tema dice en su exposición y lo ha repetido también en su intervención no se ha establecido la priorización de aquellos pacientes polimedicados oncológicos en seguimiento médico o ya tratados

que los médicos de atención primaria no han sido consultados sobre las patologías de sus pacientes y el riesgo de los mismos y que por ello no están siendo priorizados en el proceso de

vacunación no hay ningún dato en el que usted pueda sustentarse para decir eso

yo ya le he comentado más de una vez consulten el documento de la estrategia donde se establece cuáles son los y las pacientes de muy alto riesgo y cuáles son los pacientes de alto riesgo

está elaborada no por una consejera ni por un grupo político sino por un grupo de trabajo técnico de vacunación covid diecinueve

con cinco actualizaciones al respecto la última el treinta está disponible en la página web de osakidetza y también si quiere

sanidad y ahí es donde se describen cuáles son las condiciones que predisponen a las personas a un mayor riesgo de enfermedad grave

y se comenta que deben tenerse en cuenta en la priorización para la vacunación en la revisión de la evidencia científica sabe cuál es el criterio de mayor riesgo de muerte

la edad la edad ese es el principal factor de riesgo alto

seguida eso sí con ciertas condiciones como algunas de las que usted ha hecho referenciabatg tomando todo ello en consideración y en colaboración con las sociedades científicas

de asociaciones científico médicas españolas y las coordinaciones desde el plan nacional sobre el sida se han valorado las diferentes condiciones

trasplante de progenitores hematopoyéticos trasplante de órganos sólidos y lista de espera para trasplante de órganos sólidos

hemodiálisis y diálisis peritoneal enfermedad

metastásico o con radioterapia por tumores de localización torácica con riesgo de neumonitis

primarias infección con vih con menos de doscientos células por milímetro cúbico de sangre a pesar de estar en tratamiento con

eficazmente y carga viral indetectable síndrome de down

estas personas se establece que se vacunarán entre el grupo de edad de setenta setenta y nueve si antes no lo han sido por edad y que para ello además se utilizará

con la finalidad de finalizar el proceso de inmunización en el menor tiempo posible

ya el viernes se lo dijimos lo dijimos además también a la sociedad a través de una nota en los medios de comunicación que

ochenta años explicábamos que osakidetza iba a iniciar ese fin de semana y así lo hizo la vacunación de un nuevo colectivo

este de todas aquellas personas que ya conocemos que se encuentran en estas circunstancias y también le dije

con riesgo alto y no muy alto riesgo se empezaban a vacunar de esta semana sí señora sí señora garrido sí se han empezado a vacunar

etariamente y por grupos de riesgo y para ello además permítame decirle

cuenta con la información centralizada sobre cada una de esas personas de manera que puede identificarlas

señora consejera le voy a coger la palabra porque si ustedes tienen el listado y la relación de personas de alto riesgo personas con enfermedades crónicas estamos hablando de personas de alto riesgo no me haga trampas porque yo sé lo que dice la estrategia en relación a las personas de muy alto riesgo no estamos hablando de las personas de alto riesgo

enfermos pluripatológicos epoc diabetes cardiovasculares cáncer metabólicos

inmunodeprimidos estamos hablando de esos pacientes lo que me parece ya preocupante es que usted me diga

si ya han empezado a llamar esta semana siendo pacientes de alto riesgo o

y me va a decir que la estrategia de vacunación viene de la comisión nacional de salud pública sí pero ustedes tienen competencias en planificar un proceso de vacunación

y como aquí ustedes han querido priorizar con determinadas vacunas

que me parece muy bien pero usted lo que tiene que quedar claro es que usted no ha priorizado a los pacientes de alto riesgo con enfermedades crónicas en euskadi

que lo vamos a comprobar me está diciendo que ha empezado esta semana cuando la vacunación empezó en el mes de diciembre

que me diga que hasta esta semana estos pacientes que realmente están

por su especial situación personal y de enfermedad de la enfermedad y la situación que están en una situación crónica claro usted me dice es que no conozco el testimonio yo le puedo mandar le puedo decir que le llame

pero una lista porque es que es lo único que nos preguntan en la calle es que a los que estamos en el tema

que le preguntan oye yo estoy con esta enfermedad soy enfermo crónico

osakidetza llamo a osakidetza que no tienen los datos llamo a mi médico que si no los puede dar la información no está hombre señora consejera esto está pasando

claro que esto me lo dice hoy aquí porque el miércoles no lo dijo en la comisión

urge dar ya una respuesta aunque sea tarde aunque sea tarde a este colectivo a las personas de alto riesgo en euskadi que hasta ahora no han tenido noticias de osakidetza en relación a su vacunación porque no se les ha querido priorizar

un listado de muchísimas personas en esta situación yo tengo su testimonio yo se lo traigo si quiere tengo su testimonio fíese también y usted respeto que tenga mucha información como consejera con su departamento

hacen llegar a otras personas en relación a este tema

que la gente no salga de sus casas durante también periodos largos que eso tiene también repercusión en otras cuestiones y repercusión también en la salud por lo tanto hay que proporcionarles a este colectivo seguridad seguridad

se puede en relación a contagiarse o no contagiarse pues si se vacuna obviamente pues se puede paliar

de muchísima indefensión señora consejera luego me dice lo de que coincide

hablando de que las comunidades autónomas tienen que tener herramientas suficientes desde hace un año

este año sumarse a la petición del partido popular de que era necesario modificar leyes concretas

adoptar las medidas pertinentes fuera de un estado de alarma las medidas

no están dando resultados y estamos donde estamos en el ranking de los contagios de toda españa con capitales de provincia arriba no están dando resultado

que vean dónde están los problemas y que pongan las soluciones correspondientes besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea

que no las haga y sobre todo que no se las haga a la ciudadanía no

usted no escucha qué tipo de vacuna es la que necesitan el grupo de pacientes que usted está diciendo ahora

situación usted ahora aquí pretende arrogarse como defensora

y esos otros grupos a los que usted dice o ha dejado caer que hemos vacunado antes priorizando a estas personas no lo han sido con este tipo de vacuna señora garrido

porque se lo he explicado en numerosas ocasiones en la comisión de salud tipo de vacuna tipo de personas a las que se les debe aplicar esa vacuna por el bien de su salud

cuál es el mayor riesgo de muerte o situación de gravedad

la edad la edad y a ese colectivo qué se le debe aplicar

cumpliendo con la vacunación de esos colectivos que eran los más vulnerables y claro que le vuelvo a repetir

cuando se ha bajado a la edad de ochenta hacia abajo

gran número de ellos se ha priorizado a los de muy alto riesgo que sí están muy bien identificados por osakidetza y

de muy alto riesgo se los vuelvo a repetir si quiere y están perfectamente identificados se lo digo y no solo eso sino además

pero que está respetada por todas las comunidades autónomas

en ningún momento hacer ninguna ninguna aportación respecto a su modificación

de a esos de muy alto riesgo nosotros estamos incorporando a otro grupo que son los pacientes pluripatológicos o pacientes crónicos complejos que también están identificadas por parte de osakidetza y así está

y así se hace la distribución de las vacunas

y no lo olvide no lo olvide que a más vacunas disponibles mayor porcentaje de población alcanzamos a vacunar de forma rápida

vacunas en la medida que están llegando no solo para ese colectivo de personas que usted señala sino para el conjunto de la sociedad

de verdad que le pido que le pido que contribuya cuando nos dice que nos entiende que hay confusión que cambiamos de criterios no contribuya

a confundir a la población sino que contribuyamos seriamente a que podamos seguir como hasta ahora en el momento que tenemos vacunas a poder administrarlas

y priorizando como hasta ahora a los más vulnerables eskerrik asko eskerrik asko sagardui andrea gai zerrendako

gracias presidenta consejera consejero señorías buenos días de nuevo

de algunas dudas que quedan el desarrollo y la celebración de una fase

de la eurocopa en bilbao es una noticia importante era una noticia importante era un reto organizativo una oportunidad de promoción de bilbao del país vasco y hoy parece que nos encontramos con malas noticias con

y usted nos dirá pero los medios de comunicación anuncian malas noticias no bilbao es una de las doce sedes europeas para disputar esa fase final de la eurocopa

instituciones políticas municipales y

hace unos años lógicamente el año pasado no se pudo celebrar

y en diversas ciudades importantes

y garantizado su condición de sede y bueno parece que bilbao

se le ha pedido por parte de la uefa al país vasco

la información de que dispone para garantizar la presencia de público y parece que no ha habido cambios en relación con las exigencias anteriores

esencialmente la celebración y la condición de sede de bilbao

se han formulado de forma asumible o sea que hay unas cuantas ciudades la última de ellas la misma roma que también se le pidió una ampliación de la información la dio y parece que se confirma

de la eurocopa de la fase final de la eurocopa hoy sale a colación de que sevilla en los medios de comunicación que sevilla sustituirá a bilbao bueno no sabemos todavía fijo esa cuestión

también la federación española de fútbol está buscando una nueva sede para la celebración de los partidos de la eurocopa que en principio se iban a disputar en bilbao

las condiciones del gobierno vasco se dice hacen inviable la asistencia de espectadores a san mamés según informaciones federativas en relación con lo que se ha manifestado

se pronunciará igual lo hace antes o igual lo está haciendo ahora o igual lo ha hecho ya y yo no me he enterado pero ha dado el plazo hasta el diecinueve para mejorar y ampliar los informes que

entonces en ese sentido ahí está la cuestión nosotros a la vista de la situación ante la

europeo de ese día y la situación que

también del alcalde de bilbao del presidente de la federación española de fútbol

saber qué propósitos son los que tienen los definitivos de su departamento del gobierno vasco en relación con la celebración

de la eurocopa una eurocopa es una oportunidad magnífica esa fase final de una eurocopa para una ciudad y

que no se puede perder habrá garantías que se puedan aplicar en relación con la seguridad que todos queremos hemos visto otros ejemplos

bilbao el país vasco en junio y bueno y queremos saber

suyo y de su gobierno en relación con esta situación que los medios de comunicación

van describiendo muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

legebiltzarkideok sailburua barrio jauna el propósito definitivo del gobierno vasco ha sido y es que bilbao sea una de las sedes

que acogerán la eurocopa entre junio y julio y es también nuestro propósito que este evento deportivo se desarrolle de acuerdo con la situación de la pandemia y con las normas sanitarias que estén en vigor en ese momento nuestro propósito es que la eurocopa se celebre de la forma más segura posible tanto para la ciudadanía vasca

local y foráneo que esté relacionado con la organización de la eurocopa y la celebración de sus encuentros desde que el dieciocho de septiembre de dos mil catorce

al estadio de san mamés y a la ciudad de bilbao como una de las doce sedes en las que se iba a disputar la eurocopa dos mil veinte el ayuntamiento de bilbao la diputación foral de bizkaia y el gobierno vasco junto con el athletic

han trabajado codo con codo con la uefa y con la federación española de fútbol

la celebración de la eurocopa en bilbao han sido siete años de negociación y trabajo en los que las instituciones vascas han llegado a acuerdos

los requisitos que se han planteado esta actitud de colaboración se ha mantenido en todo momento y ha sido ratificada de forma reiterada y pública por el comité

ceferin señor barrio

nuestra decisión siempre ha sido consecuente con los compromisos adquiridos y recogidos en los contratos que se han suscrito por parte de las instituciones vascas

nos hemos dedicado a trabajar para cumplir nuestro compromiso no ha sido un camino fácil y la última gran dificultad nos lo ha impuesto la pandemia que obligó a la uefa a posponer la celebración de la eurocopa dos mil veinte

sobre la nueva fecha que preferíamos para su celebración con dos alternativas diciembre de dos mil veinte o junio de dos mil veintiuno habida cuenta de la incertidumbre existente en aquel momento y como mejor opción para asegurar

mostramos nuestra preferencia por el verano de dos mil veintiuno el dieciséis de junio del año pasado cinco días antes de que finalizara el estado de alarma en el estado español la uefa confirmó oficialmente que bilbao sería

y que había contado en todo momento con el apoyo institucional

san mamés fuera una de las sedes oficiales es obvio que nadie en el mundo pensó que la situación en abril de dos mil veintiuno fuera a ser la que sigue siendo hoy

han estado prohibidos en medio mundo había otras perspectivas para dos mil veintiuno pero lo cierto es que el invierno y la primavera

y la situación sanitaria ha traído consigo una lista interminable de suspensiones de todo tipo de eventos feriales comerciales deportivos musicales culturales o festivos eventos

cuando se celebran con la presencia de público ante el riesgo que las aglomeraciones suponen para la transmisión del virus y con el objetivo de evitar riesgos para la salud muchos eventos que se tenían que haber celebrado en los próximos meses han quedado nuevamente pospuestos se celebrarán sin público

el ejemplo más claro de esta incertidumbre son los juegos olímpicos de tokio

haberse celebrado hace un año son incontables los análisis comentarios y declaraciones sobre las condiciones definitivas de su celebración

o se disputarán solo con público local o incluso sin él por el aumento

y no estamos ante un problema deportivo o político señor barrio estamos ante un enorme problema de salud pública que afecta a todo el mundo creo que sirve de referencia y lo traigo aquí por eso que por ejemplo

compitieron el pasado fin de semana en el campeonato de europa de remo en varese italia sin público el judoca jose mari mendiola competirá este fin de semana en el campeonato de europa de judo clasificatorio para las olimpiadas sin público

disputarán a primeros de mayo el campeonato de europa de slam de piragüismo italia sin público en el campeonato del mundo de surf clasificatorio para las olimpiadas en el que participarán nuestras deportistas

y nadia erostarbe que se disputará en el salvador a primeros de junio

y en el campeonato europeo de piragüismo sprint también clasificatorio para las olimpiadas que se celebrará en duisburg alemania a primeros de junio

sin público le he citado solo algunos ejemplos internacionales

con aspiraciones olímpicas todas sin público dada la situación sanitaria en los países que he citado los organizadores han decidido

las competiciones previstas en los lugares previstos y hacerlo sin público para no añadir más riesgos a una situación sanitaria

quién sabe cómo estaremos en junio o julio hasta el momento en que la uefa ha decidido que la eurocopa debe celebrarse con público y ha exigido

garantías para esa presencia al margen de la situación sanitaria que se está viviendo o se viva en esos momentos en europa hasta este momento no ha habido dudas

y la dirección de salud pública del gobierno vasco ha respondido que la presencia de público en eventos deportivos ahora mismo

y que en junio o julio de ser posible estará supeditada a la situación de la pandemia en euskadi y en españa a la evolución de la vacunación y a la situación en que en estos momentos se encuentren nuestros hospitales

y es lo que deberemos seguir haciendo hasta superar definitivamente esta crisis sanitaria hoy

todos los visitantes extranjeros que se desplazan de un país a otro deben cumplir una serie de condiciones cuarentenas o realización de pruebas diagnósticas

el uso de mascarilla es obligatorio y general salvo en el momento de practicar ejercicio físico hoy se deben evitar las aglomeraciones

desde las instituciones públicas vascas hicimos un esfuerzo para permitir la presencia de público en eventos deportivos

fue posible al inicio de la temporada pero la situación sanitaria que hemos vivido desde el pasado mes de octubre ha llevado a nuestros responsables técnicos sanitarios a proponer su prohibición

a las empresas de pelota y a todos los clubs de todas las especialidades tengo encima de la mesa peticiones

para permitir el acceso de público a los estadios vascos tengo también la petición de la federación vasca de automovilismo del barakaldo de fútbol del bidasoa bera bera y zuazo de balonmano del baskonia

o de las empresas de pelota y remonte señor barrio la opinión técnica de los responsables de salud del gobierno vasco es que en esta situación

en las gradas en eventos deportivos ojalá pronto podemos encontrar una situación más favorable que la actual que permita al público aunque sea con restricciones volver a los acontecimientos deportivos

pero dependerá de la situación sanitaria eskerrik asko eskerrik asko

gracias presidenta gracias señor zupiria señor consejero

bucarest bakú glasgow copenhague

han analizado la situación y habrán tomado una serie de medidas no para garantizar precisamente que no haya

le pregunto si no han valorado en relación con lo que han hecho otras ciudades europeas que van a ser

público una serie de medidas que se puedan garantizar todos sabemos

estamos hablando del once de junio estamos hablando de que se puede organizar e implementar actuaciones

además de las restricciones que van a ser clarísimas en relación con el aforo

ciudades se puede organizar de una manera perfecta como el acceso

las estancias las distancias no cabe ninguna duda de que de las protecciones y además la posibilidad incluso de establecer sistemas de acceso con garantías

o sea que yo creo que es una posibilidad que existe y que se podía llevar a cabo precisamente para facilitar el hecho de que no solamente este sino que otros eventos y otras actividades se puedan ir desarrollando ese es el elemento fundamental es decir que podía haber

esa dedicación esa actuación por parte del gobierno el ayuntamiento de bilbao y de quienes organizan para facilitar

en barcelona un evento de cinco mil personas en un concierto a puerta en el palau sant jordi cinco mil personas un concierto de

y ese sí que es cierto que tendrían muchas cosas que decirse y que ponerse en entredicho ahí no había distancia social instancia personal

bien organizado esa cuestión y vuelvo a decir

que parece que sevilla sí que lo va a garantizar y eso es un elemento fundamental porque eso nos hace ver que bueno que estaba cerrado organizado

son esas condiciones lógicamente si no las aceptas o la cosa cambia en relación con se pactó pero bueno hay condiciones también para estudiarlas pero el asunto es que es una oportunidad perdida sería una oportunidad perdida y por emplear una

que con la expectativa de esa situación hosteleros

con un poco más de retroceso económico incluso igual alguna especie de reputación del país vasco de que a veces

no somos capaces de sortear algunas dificultades que otras ciudades vuelvo a decir porque no somos los únicos que otras ciudades

del mundo donde desde luego no van a dejar las cosas se hagan de cualquier manera es decir

yo creo que denota un poco de falta de interés en relación con este tema y con aplicarse para hacer las cosas bien y para que ese ámbito

y en otros cultural que requieren público se puedan ir desarrollando de poner en marcha mecanismos

yo le pediría un último esfuerzo a las instituciones al gobierno vasco para que amarren

y que se tomen las medidas para garantizar la salud en la distancia los accesos se puede hacer estamos hablando de cosas

que volvemos a decir que se va a vacunando cada vez más y esperemos que además tenemos

en relación también con lo que son defensa de necesidades económicas de aspectos económicos que bueno que se van a ver lesionados en esta insatisfacción muchas gracias

hace muchos meses que anda un runrún diciendo que no tenemos interés verdadero

se celebre en bilbao solo hay una razón por la que hasta el momento no se ha disputado en bilbao se llama covid

la uefa ha valorado positivamente el detalle y la calidad de la información que hemos aportado

la que se han fijado las condiciones sanitarias en las que debería celebrarse la eurocopa con público es probable que no sea suficiente

sus razones económicas y los compromisos que tiene adquiridos por patrocinios costos etcétera para lo que sí o sí necesita público

qué habría hecho usted nosotros teníamos dos opciones una era decir que sí a cualquier cosa y que luego

y otra es ser serios y decir en qué condiciones

y lo hemos dicho claramente y han agradecido nuestra información es una nueva condición en una situación inesperada

cambiar de opinión pues ya nos lo comunicarán mientras tanto y hasta ese momento bilbao sigue siendo una de las sedes oficiales de la eurocopa dos mil veinte que se celebrará por la covid en junio o julio de dos mil veintiuno

ciudades que como bilbao han condicionado la presencia de público a una determinada situación sanitaria en el caso de dublín incluso han descartado esa posibilidad dejando de lado cualquier posibilidad de presencia de público según la información que uefa ha hecho pública san petersburgo rusia en rusia perdón

han confirmado un cincuenta por ciento de capacidad budapest quiere permitir el cien por ciento

el gobierno vasco está en el grupo de los que trabajan para que bilbao sea una de las doce sedes europeas que acogerán la eurocopa entre junio y julio

que este evento deportivo se debe desarrollar de acuerdo con las normas sanitarias generales y concretas

tanto para la ciudadanía de bilbao y de euskadi como para las personas que eventualmente nos puedan visitar por ese motivo y a cuenta del posible traslado

española de los partidos que deben jugarse en bilbao por compromiso y por contrato

quiero recordarle que como consecuencia de un acuerdo adoptado de forma coordinada el pasado mes de octubre en la comisión interterritorial de salud española cito textualmente no

en eventos deportivos celebrados en el marco de competiciones internacionales de fútbol y baloncesto de carácter profesional al menos mientras dicha asistencia no esté permitida para competiciones profesionales a nivel nacional situación que a día de hoy

no se produce no sé si alguien sabrá cuál será la situación el día catorce de junio eskerrik asko eskerrik asko

gracias al empeño de las organizaciones a lo largo de estos meses de pandemia el sector cultural ha dejado claro que acudir a conciertos y eventos culturales es seguro tanto es así que el propio gobierno vasco ha organizado conciertos o va a organizar conciertos con hasta seiscientos asistentes pero todavía hay algunos aspectos que no han sido abordados

pero también está el derecho a la creación y a la expresión cultural por eso señor consejero ante un futuro incierto

andrea angulo jauna desde el pasado trece de marzo de dos mil veinte

tal y como hemos recogido en el programa de gobierno para esta legislatura

y lo es por dos motivos por un lado porque la riqueza cultural y social de un país radica en buena parte en su capacidad de crear y producir cultura y en segundo lugar porque estamos hablando de una actividad que también tiene efectos y consecuencias

las convocatorias del departamento de cultura del gobierno vasco son la principal fuente

de la creación cultural en euskadi estamos cerrando el balance de dos mil veinte hemos mantenido todas las convocatorias de subvenciones adaptándolas

hemos destinado ocho coma seis millónes de euros a través de nuestras convocatorias a la creación y producción en literatura música artes escénicas

y otras transversales lo que ha permitido apoyar en total cuatrocientos sesenta y seis proyectos culturales independientes eskerrik asko

y sobre las que ya preguntamos en su momento pero hoy le preguntamos sobre el derecho a la creación y la diferencia es que mientras algunos espacios privilegiados

otros más desafortunados se han visto apartados no solo de las ayudas económicas tan imprescindibles en estos momentos

tocando o ensayando y me estoy refiriendo a las bandas a los coros y a los demás grupos culturales

en donde sus componentes tienen que compaginar su vocación artística con otro trabajo esto es así en el ochenta por ciento de los grupos musicales

que la cultura está sufriendo en estos momentos la sindemia cultural se está llevando por delante infinidad de espacios de creación no solo galerías museos y salas

la posibilidad de que muchos talentos tengan la oportunidad de mostrar su trabajo como en otras actividades en la música es necesario diría que imprescindible el ensayo

y a la situación económica en la que se ha quedado el sector y la imposibilidad de actuar

la discriminación a interprofesionales y amateur no se acaba de entender mientras algunas personas

y que la cultura no pierda más de lo que ha perdido desde la administración no se les está permitiendo

en el deporte donde tampoco se entendía esta discriminación la situación cambió se entendió el beneficio y se aplicaron protocolos y ahora se puede hacer deporte en grupos de cuatro esto no es así en el sector cultural

a seguir esperando a que la situación cambie perdiéndose con ello las ganas de seguir y es que señor zupiria la cultura no puede ser considerada solo un entretenimiento

hay una diferencia importante además entre la cultura profesional y la no profesional y una de las grandes diferencias es que en uno de los casos sus agentes dependen de esa actividad

y vivir el año veintiuno está siendo también un año incierto para los profesionales de la actividad cultural que es para quienes el departamento normalmente trabaja y no voy a referirme a otras cuestiones que tienen que ver más con el ámbito sanitario no me considero yo la persona más competente para hacerlo no lo voy a explicar yo a usted por qué personas que no son profesionales no deberían juntarse en grupo

este año por las razones expuestas de cara al sector profesional

pero creo que adquiere una mayor la línea especial de ayuda a personas autónomas empresas y entidades profesionales de la cultura que sufrieron caídas de ingresos

en esta convocatoria de ayudas directas cuyo plazo de presentación finalizará mañana se han registrado hasta la fecha trescientos sesenta y tres solicitudes